los trabajos previos han finalizado esta semana y actualmente se encuentran en fase de presentación de enmiendas

de quienes asistieron a la comisión tenemos la sensación de que efectivamente

un elevado acuerdo con la globalidad de la ley ante la necesidad de abordar un acuerdo entre los grupos parlamentarios para agilizar los trabajos parlamentarios con el objeto de poder aprobar la ley de turismo antes de finalizar la legislatura quisiéramos conocer tanto los objetivos que se pretenden abordar con la misma

sobre si hay realmente razones urgentes que aconsejan su aprobación antes de la finalización de la legislatura y cuáles podrían ser las consecuencias de la no aprobación muchas gracias

lege egitasmo honetan por tanto hemos escuchado a todos los que nos han querido contar algo hemos aceptado las alegaciones que consideramos oportunas el sesenta y uno por ciento

el que haya discrepancias no supone que esta ley sea peor el texto presentado vela por la oferta turística porque sea de calidad porque exista seguridad jurídica

defraudado y desde luego la no aprobación sería una mala noticia para

la última palabra la tiene esta cámara el parlamento evidentemente

decir que es importante trabajar para que esta ley de turismo vea la luz antes de finalizar la legislatura

el período de esta cámara no significa poner ningún tipo de presión sobre la misma sino todo lo contrario nuestra voluntad de colaborar para que sea una realidad

pero además queremos agradecer el trabajo que se ha hecho desde el sector un sector que ha trabajado codo con codo con la administración para poner en marcha este proyecto de ley

estos representantes además aproximadamente la mitad como decía el señor tellería han declinado

hacer ningún tipo de comparecencia alegando no premura de tiempo sino que ya han hecho el trabajo suficiente en la mesa y que están de acuerdo con la ley presentada y que lo que de alguna forma nos demandan es que se apruebe lo más rápidamente posible qué es lo que pone o cuáles son las razones que

pues que es importante disponer de una nueva ley después de una ley que tiene más de veinte años desde que se ha aprobado desde el año mil novecientos noventa y cuatro

nuevas formas de prestación de servicios que las personas que nos visitan son diferentes desde luego diferentes servicios y diferentes actuaciones al sector turístico actual que la forma de diseñar los viajes es diferente y tenemos que regularla

tales como las empresas de restauración que no siendo turísticas per se

por tanto diría que una ley que salga de esta cámara mejor que la que ha entrado con las correspondientes enmiendas con las aportaciones de todos los grupos

es lo que el sector nos está demandando y lo que tenemos la obligación de atender de la forma más adecuada posible eskerrik asko guztioi egiten duzuen lanagatik eskerrik asko

aumento de casos eso sí hay más concienciación y mayor visibilidad y por lo tanto afloran más casos el hecho de que afloran y se denuncian antes en esta legislatura emakunde ha creado un área específica para la eliminación de la violencia contra las mujeres hemos puesto en marcha el programa

por primera vez un plan de coeducación para trabajar la igualdad y la prevención en los centros educativos el programa nahiko en primaria y beldur barik en secundaria trabajamos y hemos firmado también un acuerdo con los medios de comunicación y las agencias de publicidad en la comisión begira para evitar estereotipos y perspectivas sexistas contamos con servicios específicos valorados en más de diez millónes de euros para asistencia jurídica gratuita juzgados de violencia de género ayudas a las víctimas teléfono de atención que usted ha citado

en cualquier caso y tal y como denuncié en el primer consejo de gobierno de este curso político en donostia y en cuantas ocasiones propias lo hemos dicho

persiste y debemos continuar trabajando para erradicarlo y hasta erradicarlo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna urrea andrea zurea da hitza

legislatura en materia de lucha para erradicar las violencias machistas yo quiero que simplemente se fije en una imagen doce mil personas aquí mismo en gasteiz doce mil personas

por su inacción y por su falta clara de voluntad política a la hora de erradicar las violencias machistas y esto es así señor lehendakari esto es indiscutible

una prioridad política no es una prioridad política y se lo voy a resumir muy rápidamente no es una prioridad política porque lo vemos en los recursos usted dice que el dinero

es fundamental contar con los medios necesarios para ello dar legitimidad a emakunde que es quien lidera en esta comunidad autónoma las políticas de igualdad ni legitimidad porque ha habido en múltiples ocasiones en las que se ha quedado sola con declaraciones porque no ha habido por parte de este gobierno ningún tipo de apoyo por otra parte seis millónes de euros de presupuesto para emakunde de un presupuesto total de trece mil millónes de euros es que las cifras

un plan de coeducación un plan de coeducación que se vendió a bombo y platillo ante los medios de comunicación pero que es un absoluto fracaso porque

maravilloso pero que no se cumple es un texto que se ha aplicado a cincuenta centros escolares que hemos conocido los presupuestos de cien mil euros lo que equivale a dos mil euros para cada centro escolar

que en diez horas dígame usted si podemos cambiar los valores y transitar hacia esa igualdad que tanto nos dice el gobierno porque

que aumentan las desigualdades sociales y por tanto las desigualdades de género que van en detrimento de la población y sobre todo en detrimento de la vida de las mujeres que nos permite

vulnerables a la hora de generar violencias porque hay que hablar de cuestiones muy concretas la violencia no es solo un maltrato una llamada por acoso

porque las políticas que realiza este gobierno ahondan en nuestra precariedad y eso genera que tengamos que volver a los hogares y que tengamos que sufrir las consecuencias derivadas de estas políticas

lanbide en múltiples ocasiones y lo conocerán ustedes cómo se siguen manifestando las organizaciones sociales porque lanbide no garantiza criterios claros

que tendrían que tener acceso por ser víctimas de diversas violencias hay muchas cuestiones que están encima de la mesa que ustedes no han atajado yo vuelvo a repetir en esta cámara que a ustedes señorías les importa un carajo erradicar las violencias machistas

señora urrea creo recordar que fue la primera ocasión en

la que tuve la oportunidad de responder también a una pregunta suya en relación a emakunde a la violencia contra las mujeres utilizó el mismo tono y el mismo discurso exactamente que el que hoy ha hecho en aquel momento le contesté de manera no lo voy a hacer hoy creo que se descalifica usted y lo peor de todo es que descalifica

desde luego en lo que pueda ser la actuación contra la violencia que sufre el género femenino ni usted ni su grupo parlamentario va a hacer más que lo que pueda hacer el grupo parlamentario nacionalistas vascos ni este gobierno ni el resto de los grupos parlamentarios presente en la cámara

los programas y las inversiones que están en marcha y tienen recorrido de mejora

le he dicho en mi primera intervención lo que ha sido nuestra concepción de violencia estructural que no hay más casos pero que sí afloran más casos

es también de educación de cultura de respeto de seguridad de justicia y en todo eso está actuando este gobierno según las iniciativas

y mientras haya una sola mujer que sufra la violencia machista ni las instituciones ni la sociedad pueden darse por satisfechas plan sexto de igualdad para la mujer asisto a todos los consejos de dirección de emakunde como también a la comisión interdepartamental eskerrik asko

lehendakari sabemos que no hay oasis vasco tampoco en materia de corrupción tramas ilegales comisionistas o falta del control del dinero de todos lo sabe este parlamento donde hemos investigado políticamente sobre estas cuestiones

hemos aprobado recomendaciones para impedir que esas conductas se repitan y hemos dejado en manos de los jueces la determinación de responsabilidades penales mercantiles o administrativas lo sabemos aunque su grupo nunca haya querido entenderlo despejando todos los casos exclusivamente a la vía judicial pues bien existe un procedimiento abierto

para acusar a veintiséis personas de cohecho asociación ilícita blanqueo de capitales y tráfico de influencias el anterior gobierno el gobierno de patxi lópez se personó como acusación particular

su gobierno mantuvo esa personación a punto de abrirse el juicio oral la fiscalía que representa el interés público pide para los veintiséis acusados cuatrocientos cincuenta y ocho años de prisión los servicios jurídicos del gobierno por su parte han evitado hacerlo alegando que dado el carácter exhaustivo de la calificación provisional realizada por el ministerio público

en relación con la calificación penal de los hechos enjuiciados la pregunta que le hago es muy sencilla lehendakari con el calificativo de

tenemos que entender que la representación legal del gobierno asume en su totalidad la pena solicitada por la fiscalía eskerrik asko pastor jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi señor pastor los criterios con los que el gobierno vasco actúa ante los tribunales son siempre los que marcan sus servicios jurídicos

desde el primer momento en el que este gobierno intervino en el proceso judicial hasta hoy y se han centrado

del país vasco ese ha sido y sigue siendo el interés público a defender por el gobierno vasco en este caso

que han sido mal utilizados la personación del gobierno vasco en este procedimiento tuvo lugar en calidad de perjudicado y cito textualmente del escrito de personación de trece de julio del año dos mil diez

a los legalmente previstos y hay que reconocer que en este punto los servicios jurídicos del gobierno vasco actúan en sintonía con la preocupación que siempre ha prevalecido en esta cámara

me gustaría recordar a este respecto que la primera recomendación de entre las que esta cámara aprobó el año dos mil doce para poner fin a la comisión de investigación sobre el asunto llamado de miguel hablaba literalmente de aplicar de inmediato al objeto de mitigar el quebranto económico causado a las arcas públicas

ese y no otro sigue siendo el criterio que guía la actuación de los servicios jurídicos del gobierno vasco en el caso al que se refiere la pregunta

los procedimientos legales que resulten necesarios para reparar el quebranto económico que hayan podido provocar en la hacienda general del país vasco los hechos que eventualmente los tribunales consideren

tomó la iniciativa de pedirles a los encausados que

en producirse tal hecho a instancias por cierto del portavoz señor egibar y no suya

la acusación particular es verdad que no tiene porqué secundar en su totalidad la petición de penas de la fiscalía pero me reconocerá que entre solicitar cuatrocientos cincuenta y ocho años de cárcel y no pedir ninguno hay mucha distancia demasiada distancia eso

resulta cuando menos contradictorio sino directamente opuesto y no parece muy beligerante a la hora de defender los intereses que nos ha señalado todavía hoy parece olvidar que los hechos se conocieron porque hubo una denuncia particular que mientras el señor urkullu se distanciada de los acusados desde el ebb su portavoz se abrazaba a ellos

el partido que presidía cargó en este parlamento contra quienes quisimos indagar

y que ahora los servicios jurídicos del gobierno que dirige evitan definir el alcance de la responsabilidad penal que pudiera derivarse de su enjuiciamiento

salvo que se quiera aparentar que se hace lo que en realidad no se hace creo que ha perdido usted señor lehendakari una nueva oportunidad para despejar dudas y desmarcarse de verdad

con la sospecha de que la actuación de este gobierno pudiera tener algo que ver con la afiliación política de los encausados

de que la afiliación política de los encausados tiene mucho que ver con la postura que mantiene el gobierno vasco eskerrik asko pastor jauna erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor pastor ya veo que no se ha leído con detenimiento el escrito de la acusación del fiscal los titulares de prensa sí pero el escrito de la acusación no pero insisto en este sentido los servicios jurídicos son

cuando actúa ante los tribunales en las causas en las que está personado en todos yo confío plenamente en su capacidad técnica y espero que nadie ponga en cuestión ni su profesionalidad ni su buen hacer las instrucciones políticas son irrelevantes a la hora de actuar ante los tribunales de justicia y las estridencias siempre son malas consejeras

se respira mejor ni por cargar las tintas en la acusación se defiende mejor y con más eficacia y garantía el interés público de reparar el daño que eventualmente hayan podido causar a la hacienda general del país vasco los gastos que un tribunal pueda considerar ilegales

la personación del gobierno vasco en el procedimiento al que se refiere la pregunta es una personificación finalística que está encaminada a la recuperación de los fondos públicos que el tribunal competente declare que fueron indebidamente abonados así ha sido desde el principio y así sigue siendo ahora y esa es por otra parte la idea principal

en una resolución que aprobó el dieciséis de abril de dos mil quince por ejemplo instaba al gobierno a personarse

invitándole a emprender y la cita es literal cuantas medidas sean necesarias para recuperar los fondos públicos concedidos por dicho gobierno respecto a los que una sentencia determine que se ha hecho un uso

la frase que acabo de leer recogía textualmente el tenor de una enmienda precisamente del grupo parlamentario socialista que estaba en sintonía con este planteamiento por todo ello he sostenido y ahora reitero

los criterios del gobierno vasco son claros son coherentes son eficaces

esto no significa que haya otros intereses públicos que se puedan defender
para eso está precisamente el fiscal en el ejercicio de las competencias del ciento veinticuatro de la constitución eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako laugarren puntua

señores consejeros tenemos un problema muy serio en pasaia

en el puerto de pasaia en relación concretamente con la construcción de la lonja de pescado una lonja de pescado que fue presupuestada en su día

pero que hoy las voces más optimistas dicen que el desfase

euros casi dos años después casi dos años después del inicio de esas obras no sabemos ni el estado de las mismas no sabemos cómo y en qué se han gastado esos veinte millónes de euros y nadie ha justificado ese desvío

y tampoco sabemos cuándo van a terminar las obras y cuándo se va a inaugurar la lonja de pescado entre las cosas raras que sabemos

conocía este desfase desde mediados del año dos mil catorce y que no fue

cuando informó al consejo de administración del puerto de la autoridad portuaria entre las cosas preocupantes sabemos también que la fiscalía ya ha actuado y que ha advertido en un escrito al juzgado

entre las que cita la fiscalía cohecho tráfico de influencias administración desleal

entre otros la pregunta es señora consejera qué va a hacer eskerrik asko sémper jauna

legebiltzar mahai buru andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on en primer lugar señor sémper le debo señalar y dejar constancia de ello que el puerto de pasaia es un puerto de interés general y por tanto es un puerto de competencia de la administración general del estado que conforme a la ley de puertos del estado funciona en régimen de autonomía y es a puertos del estado a quien compete y corresponde la coordinación y el control de la eficiencia del sistema portuario

organismo público que es tiene plena capacidad de obrar y depende del ministerio de fomento a través de puertos del estado conforme a los principios generales de autonomía funcional y de gestión una vez aclarado esto voy a relatar brevemente las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad portuaria por el presidente del consejo de administración

la gestión realizada en el aspecto que usted apunta en este sentido cabe señalar el trámite de expediente de responsabilidad patrimonial activado para que con un apoyo técnico especializado se permita clarificar y responder a todos los aspectos del informe

contando para ello con el pronunciamiento expreso del órgano de supervisión de puertos del estado que ha sido el encargado de comprobar los aspectos relativos los aspectos estudiados que se están estudiando en este expediente responsabilidad patrimonial pero no se ha quedado aquí únicamente la actuación

reitero por unanimidad en la sesión del diez de marzo adopta una serie de acuerdos en los que leo un extracto leo de manera textual en el que se solicita por una parte al organismo público puertos del estado que realice una auditoría íntegra desde los puntos de vista económico financiero técnico y legal en relación con las obras de las nuevas instalaciones en el área pesquera de pasaia y me detengo en el punto sexto del apartado segundo que señala precisamente

se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad judicial de este acuerdo se da traslado al presidente de puertos del estado con una certificación del acuerdo del consejo firmado

y por la abogada del estado a partir de ahí con posterioridad a ese acuerdo por unanimidad del consejo de administración se toma la iniciativa de sin aún disponer de la auditoría de puertos del estado solicitada y contraviniendo ese acuerdo por unanimidad del consejo someterlo de nuevo a votación del consejo a instancias de la misma persona y llevarlo a la fiscalía a pesar de que también en esa votación que se estima

se acuerda continuar con los acuerdos que habían tomado

en el acuerdo inicial por unanimidad por tanto a la luz

por parte de los órganos de gobierno de la autoridad portuaria creo que se está trabajando con prudencia y responsabilidad y se está dando curso a los acuerdos tomados en el seno de ese consejo por unanimidad eskerrik asko

que la abogada del estado haya que dimitir porque alega y porque denuncia presiones

dimitir porque denuncia presiones que izaskun iriarte que le sonará señora consejera que es su viceconsejera

apoyo técnico especializado diga en relación a la auditoría que encarga el presidente la autoridad portuaria en relación a esa autoría independiente que tiene que velar y tiene que fiscalizar cómo se han hecho los trabajos y a qué se ha dedicado el dinero diga

estamos trabajando en la actualidad en la elaboración de un trabajo de gran relevancia y lo están haciendo muy bien estamos muy contentos con su trabajo los investigados los analizados por esa auditoría dicen que quienes que esa auditoría despierta mucha simpatía en el propio gobierno sorprende que una asistencia técnica como es idom contratada para velar por el buen desarrollo de los trabajos haya cobrado al día de la fecha seiscientos mil euros

y que o denunció o identificó que las obras tenían un desvío preocupante y alguien no hizo nada o no lo denunció y su trabajo desde luego merece una censura y claro que es una infraestructura propiedad del estado claro que sí cedidas en su gestión al gobierno vasco que nombra al presidente a la autoridad portuaria

pero les voy a contar un ejemplo si me da tiempo de qué sucede en el consejo de administración saben quién es el alcalde de urretxu es del partido nacionalista vasco

del puerto pide una excedencia de dos años para hacer un máster relacionado con el transporte marítimo

le expulsan le echan del trabajo de la autoridad portuaria él rechaza esa expulsión saben por qué ha vuelto a ser admitido

ese acuerdo porque no se pudo reunir el consejo de administración porque otro directivo estaba esquiando fuera

el presidente del puerto de la autoridad portuaria qué pasa en el puerto de pasaia cuando ustedes tocan la gestión qué sucede
esta es la capacidad de gestión del partido nacionalista vasco eskerrik asko sémper jauna

atropellada y absolutamente incorrecta

yo le he contestado por escrito varias de las cosas que ha dicho así que no voy a entretener

las conocen en esta cámara en cuanto al escrito de la fiscalía también parece que usted tiene más información que la propia autoridad

se menciona de manera indiciaria que pueden contemplarse diversos delitos

por prensa y por lo que usted nos está diciendo y no creo que es bueno ni para la administración pública

para la administración de justicia la utilización de este tipo de informaciones y de estas cuestiones

consejeros señor lehendakari se acaba de conocer que la fiscalía de álava ha solicitado al juzgado de lo mercantil la declaración de quiebra fraudulenta de la sociedad

y solicita para sus principales promotores diez años de inhabilitación y a las empresas participantes que devuelvan quince coma siete millónes de euros recibidos como subvenciones

en la misma línea se inscribe también la postura de la abogada del estado que intenta recuperar las importantes subvenciones que otorgó el gobierno de españa

del partido nacionalista vasco también la administración concursal solicita la declaración de quiebra fraudulenta en todo este proceso el gobierno vasco no ha querido actuar seguido manteniendo que se trató sin más de un fracaso empresarial tanto la comisión de investigación que se desarrolló en este parlamento como ahora la investigación llevada a cabo en sede judicial dejan claro el enorme fiasco del proyecto hiriko

al de epsilon el otro gran sueño automovilístico del partido nacionalista vasco que solo sirvió

ambos proyectos han costado a las arcas públicas más de sesenta millónes de euros yo le quiero preguntar señor lehendakari si sigue manteniendo que

empresariales o si hay algo más detrás quiero preguntarle si el gobierno vasco va a pedir perdón quiero preguntarle si el gobierno vasco va a asumir sus responsabilidades políticas quiero preguntarle si efectivamente quieren pedir perdón también a los grupos políticos que durante largos meses hemos tratado de aclarar todo este

la verdad de los hechos ocurridos mientras el fiscal el abogado del estado y los administradores concursales consideran que se trató de una quiebra fraudulenta y reclaman penas de inhabilitación para los promotores además de recuperar las subvenciones otorgadas casi dieciséis millónes de euros desconocemos si el gobierno vasco va a tomar algún tipo de iniciativa

de españa pero que lo fue a instancias del partido nacionalista vasco en aquellas negociaciones presupuestarias absolutamente vergonzosas con el partido socialista de zapatero y también que el gobierno vasco concedió

a juicio del tribunal vasco de cuentas públicas se dieron sin garantías estos son los hechos ocurridos queremos saber por lo tanto qué es lo que va a hacer

que efectivamente estamos ante un fraude monumental y si va a reconocer que

en proteger a sus amigos que en clarificar los hechos ocurridos gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor maneiro el gobierno vasco ha afirmado que fue un proyecto fallido y personalmente así lo he reconocido

y le recuerdo señor maneiro que el caso se encuentra pendiente de juicio y corresponde al juez dictar sentencia no le corresponde al gobierno ni tampoco a usted ni a nosotros juzgar o prejuzgar los hechos lo importante son los hechos

personado en las diligencias de investigación abiertas por el juzgado número tres de vitoria gasteiz personado también la vía mercantil en defensa de los intereses económicos

y lo seguirá haciendo hasta su esclarecimiento definitivo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

a regañadientes tuvo que ser este parlamento el que le instara a personarse en la causa

una sesión de control dijo al fin y a regañadientes que sí se iban a y a reclamar los perjuicios provocados por este fiasco pero durante largos meses el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco negó que hubiera un fraude usted lo ha calificado como

es mucho más que eso es la defensa por parte del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco de los intereses particulares de determinadas personas afines

esta es la realidad de los hechos ustedes defienden a los suyos y perjudican el interés general ustedes votaron también en contra de la creación de la comisión de investigación es
el amiguismo del pnv de toda la vida eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna

señor maneiro menos mal que vamos avanzando poco a poco pero vamos avanzando ha pasado usted de afirmar que el gobierno vasco no ha hecho nada de que no ha querido actuar en todo este proceso a decir que ha actuado de manera insuficiente bueno yo creo que oculta la evidencia que lo niega

mire usted en la justificación afirma que el caso epsilon solo sirvió para el enriquecimiento de determinados personajes muy ligados todos ellos al nacionalismo y oculta la sentencia que niega esta afirmación el caso epsilon ha sido juzgado por la audiencia de álava y en el año dos mil catorce condenó a su ex responsable

la audiencia considera a esta persona responsable de la quiebra de la empresa usted afirma que el proyecto hiriko igual que epsilon

y oculta la evidencia que lo niega señor maneiro dice que las empresas que participaron recibieron quince coma siete millónes de subvención oculta a pesar de que algo ha dicho en relación a lo que son las subvenciones del gobierno español oculta que

proceden del ministerio de ciencia e innovación del gobierno español los años dos mil diez y dos mil once y como usted comprenderá a pesar de su acusación señor maneiro

administrativos rigurosos y profesionales para la concesión de este tipo de ayudas desde luego no creo que adopte sus decisiones y otorgue sus subvenciones para dar respuesta a ningún sueño de ningún tipo de nadie mire se lo voy a decir con absoluta claridad

firme completo y permanente y también se lo voy a decir con absoluta rotundidad el compromiso de este gobierno es también firme

y permanente en el respeto a los procesos y procedimientos judiciales beraz argi eta garbi esango dizut jaurlaritzaren konpromiso osoa

sí gracias presidenta señor lehendakari insistimos en un asunto que en nuestra opinión tiene su importancia y es relevante es un asunto que hemos tratado en este parlamento y en el congreso de los diputados en varias ocasiones durante los últimos años es algo que en fin han rechazado también insistentemente el resto de grupos parlamentarios han sido varias por lo tanto las ocasiones en las que upyd ha pedido tanto en el parlamento vasco como en el congreso de los diputados y en otras instituciones la supresión de los aforamientos la supresión de la institución

casi dos años upyd defendió en el pleno del parlamento vasco una iniciativa parlamentaria que proponía exactamente lo siguiente proponíamos que este parlamento instara al gobierno de españa a que en el próximo proceso de reforma constitucional se eliminen los supuestos de aforamiento previstos en la constitución

parlamentarias también instábamos queríamos instar

y mientras ese proceso de revisión constitucional se produce en el plazo máximo de seis meses

en el ámbito de sus competencias todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas leyes también proponíamos instar al gobierno vasco

a impulsar en el ámbito de sus competencias todas las reformas legales que sean necesarias con el objetivo de eliminar todos los supuestos de aforamiento existentes actualmente en euskadi sometiendo a revisión en su conjunto todas las prerrogativas

proponíamos también que este parlamento instara a las juntas generales de los territorios históricos y a las diputaciones forales a impulsar todas las reformas normativas para lograr ese

era y sigue siendo y lo será en el futuro suprimir la institución del aforamiento por considerar que es una figura absolutamente anacrónica que

entre ciudadanos a unas personas se les trata de una manera y al resto de ciudadanos se les trata de otra nosotros pensamos que esto es un anacronismo que debe ser

lo llevamos al congreso de los diputados hace algunos años lo hemos mantenido en el tiempo y hemos visto que siempre el resto de grupos ha votado en contra aunque también es cierto que en los últimos meses parece ser que esta opinión va cambiando en la mayoría de los partidos políticos que vienen a reconocer que efectivamente esta institución

no tiene ningún sentido rompe la igualdad y por lo tanto hay que suprimirla esta propuesta que le he citado que fue defendida en este parlamento hace dos años no recibió el apoyo de ningún otro grupo parlamentario

decayó del mismo modo que iniciativas semejantes decayeron antes en otros parlamentos y en concreto también en el congreso de los diputados en aquella ocasión

todos los grupos criticaron contundentemente la propuesta de upyd y consideraron innecesaria la idea de suprimir los aforamientos existentes en españa que son más de

más de diez mil los aforamientos existentes en españa

de dos mil catorce se aprobó una enmienda presentada por el grupo socialista votada favorablemente por el grupo proponente y por un servidor que decía lo siguiente el parlamento vascoconsidera procedente abrir un proceso de examen

y adecuación del régimen de garantías de los cargos públicos y sus límites una enmienda claramente insuficiente en opinión de nuestro grupo aunque el compromiso de examinar y reflexionar sobre la cuestión sea algo más que nada

que vilipendió la propuesta de upyd planteada en su momento en el congreso afirmaba en una entrevista lo siguiente proponemos pasar de

a veintidós admitiendo de ese modo al menos parte de los planteamientos expuestos por nuestro partido político unos pocos meses antes

duramente durante los últimos tiempos señor erkoreka señor lehendakari las cosas parece que están cambiando o al menos hay algunos partidos políticos que quieren dar

pueden ir cambiando más allá de que todavía no se hayan producido hechos efectivos para afirmarlo

si cuando upyd propuso la supresión de los aforamientos el resto de partidos políticos tildó la propuesta de demagogia populismo o antipolítica ahora se ve con buenos ojos

ahora incluyen esta propuesta en sus programas electorales como una medida de regeneración democrática hay varios partidos políticos que nos insultaban por poner esto que ahora han

la necesaria supresión de la institución del aforamiento en fin son cosas que pasan la última vez que el asunto se debatió fue hace

sin que finalmente se aprobara nada efectivo en estos momentos en que parece que las cosas están cambiando consideramos apropiado volver a traer el asunto a debate

al propio lehendakari del gobierno vasco aquí también tenemos competencias para llevar a cabo alguna serie de reformas legales que vayan en la línea de suprimir los aforamientos que algunos de nosotros o todos nosotros disfrutamos por eso le preguntó al lehendakari sobre los propósitos de este gobierno para impulsar también desde euskadi

no es esta la primera ocasión en la que se aborda el debate sobre el aforamiento en esta cámara es cuando menos la cuarta vez en la presente legislatura

junio del año dos mil catorce hace casi dos años efectivamente en aquella ocasión

no solamente no consiguió sacar adelante su iniciativa que únicamente contó con su voto favorable

alternativamente una resolución distinta que arrancaba de una enmienda registrada por el grupo parlamentario socialista

un proceso de examen reflexión y adecuación del régimen de garantías de los cargos públicos y de sus límites pocos días después

y el lehendakari le dio su opinión en relación con la figura del aforamiento nada favorable a la misma y nada tampoco comprometida con su defensa

concluyendo su intervención es que era partidario efectivamente de abrir cuanto antes en esta cámara ese proceso de examen reflexión y adecuación que la misma cámara aprobó para sí misma después presentó una interpelación transcurrido el verano en septiembre registró una interpelación que se debatió

en noviembre el diecisiete de noviembre en esta cámara sobre idénticas bases conceptuales y desde los mismos planteamientos políticos yo tuve el honor de darle respuesta a aquella interpelación luego haré referencia a la idea que me queda de lo que

de sí el debate inmediatamente después de la interpelación registro usted una moción que retiró

en febrero de este año de dos mil dieciséis durante el año dos mil quince no ha habido iniciativas suyas sobre este particular en febrero del año dos mil dieciséis presentó una nueva iniciativa que volvió a retirar

compruebo efectivamente descansa sobre los mismos planteamientos políticos y sobre bases conceptuales idénticas a las que han inspirado o inspiraron las iniciativas del año dos mil catorce yo con estos antecedentes

a reconocerle el mérito de haber sido la persona que ha promovido el debate sobre el aforamiento en esta cámara es evidente que si usted no lo hubiera hecho muy probablemente la cámara no hubiese asistido a ese debate probablemente no hubiera tenido lugar el debate sobre el aforamiento en esta cámara si no hubiera sido por su iniciativa inmediatamente después de dicho esto permítame poner un pero a lo que acabo de decir es cierto que usted ha traído el debate a la cámara y es cierto también que lo ha hecho

insistencia y una tenacidad dignas de elogio pero no es menos cierto que lo ha hecho más como un cronista que como un parlamentario permítame que

ha promovido aquí un debate y un debate crítico en relación con la institución del aforamiento lo ha hecho

ha forzado la toma de posición de los grupos parlamentarios porque ha sometido a votación unas iniciativas perfectamente formuladas ha recabado también la opinión del gobierno vasco pero sin embargo no ha hecho algo que pudiendo haberlo hecho no lo ha hecho

directamente encaminada a promover a impulsar las reformas legislativas que son necesarias para suprimir la figura del aforamiento esto podía haberlo hecho presentar aquí proposiciones de ley iniciativas legislativas iniciativas normativas encaminadas a modificar la constitución a modificar estatutos de autonomía a modificar la ley orgánica del poder judicial y las demás normas que consagran la institución del aforamiento y sin embargo no lo ha hecho

pero esa iniciativa que le faltaba para poner en marcha de verdad haciendo uso de las facultades que tiene como parlamentario la iniciativa registrada como tal para promover esas reformas legislativas

que como un parlamentario yo he revisado el debate que tuvo lugar el año dos mil catorce el de noviembre y he comprobado que entonces efectivamente pues pusimos en común prácticamente

y además me ha dado la sensación de que teníamos un alto grado de coincidencia yo no defendí el aforamiento en ningún momento no yo

no solamente hacer referencia a los orígenes del aforamiento a su tratamiento jurídico a su sentido político y jurídico al que históricamente se le ha atribuido

a la posición que el tribunal constitucional ha venido manteniendo en relación con esta figura intenté destacar lo que tiene de positivo y lo mucho también que tiene de perturbador de patológico y de negativo no solamente desde el punto de vista

sino también desde el punto de vista de lo negativo que puede resultar para el aforado el hecho de que la doble instancia en el ámbito penal

sencillamente eliminada a todo eso hicimos referencia yo he visto que sus planteamientos de ahora son básicamente coincidentes con los de entonces yo espero que me acojo a su magnanimidad para excusarme de repetir ahora todo lo que dije ya entonces

las reflexiones que entonces formulé básicamente son las mismas que defendería ahora y puesto que están dichas y recogidas en el diario de sesiones pues no voy a insistir ahora en repetirlas una repetición que seguramente sería tediosa y no aportaría nada al debate

que dije entonces que entonces pronuncié y que no quiero dejar de repetir ahora en este momento cuatro primero el aforamiento tal y como está

jurídico español está plasmado en normas cuya reforma cuya derogación no está al alcance de este gobierno que la interpelación va dirigida al gobierno pero evidentemente

no son decretos del gobierno que el consejo puede modificar cualquier martes cuando se reúne en

la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y otras dictadas mayoritariamente por las cortes generales cuya modificación no está en manos del gobierno en segundo lugar

jurídica o la institución del aforamiento no hace falta el concurso ni tan siquiera la participación del gobierno vasco lo puede hacer esta misma cámara lo pude hacer un grupo parlamentario lo puede hacer usted mismo

una iniciativa tendente a poner en marcha los mecanismos de modificación de estas normas jurídicas que se pueden impulsar desde este mismo parlamento lo puede hacer usted sin ir más lejos y en este sentido pues no tiene mucho sentido que

inevitablemente obligatoriamente el concurso del gobierno vasco en tercer lugar el gobierno vasco no es en absoluto en absoluto partidario de mantener esta figura jurídica yo creo que el lehendakari en la pregunta aquella que usted le formuló en junio del año dos mil catorce fue claro a ese respecto y yo más claro aún si cabe en la interpelación

por la que hacía votos esta cámara en el acuerdo que adoptó en junio del año dos mil catorce es favorable a que ese debate tenga lugar en esta cámara y en otros foros

en ningún momento y en ningún momento se ha opuesto además a que

encaminada a la consecución de ese objetivo yo recuerdo que en la interpelación le daba cuenta de borrador de proyecto de reforma de la ley orgánica del poder judicial que había circulado en aquel momento

un borrador al que nosotros como gobierno vasco hicimos muchísimas alegaciones pusimos muchísimas objeciones pero sin embargo en ningún momento pusimos objeción alguna

el borrador planteara la eliminación de una buena parte de los aforamientos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y en cuarto y último lugar el gobierno vasco el lehendakari y los consejeros que integramos el gabinete no gozamos de un régimen de aforamiento particularmente privilegiado que

ni tan siquiera de manera implícita la idea de que estamos defendiendo algo que nos privilegia de manera especial el aforamiento de los cargos públicos

el veintiséis punto seis se refiere a los parlamentarios a los setenta y cinco que ocupan escaño en la cámara y el treinta y dos punto dos se refiere al lehendakari y a los miembros del gobierno ambas normas están configuradas son un calco la una de la otra están configuradas exactamente en los mismos términos por tanto el aforamiento es exactamente el mismo dicho esto bien puesto que esta cámara en junio del año dos mil catorce su voluntad de iniciar un proceso de reflexión de estudio y adecuación de esta figura jurídica el gobierno

puesto que la cámara decidió que iba a abordar esta reflexión pues el gobierno vasco escucha con atención espera con atención y en cuanto se pronuncie la cámara actuará en los términos en los que requiera la cámara por lo demás ya conoce cuál es nuestra posición

sí gracias presidenta señor erkoreka

un cronista sabe cuál es el mayor éxito de toda aquella persona que se dedica

que con argumentos mantenidos en el tiempo y defendidos con ahínco sea capaz de que el resto de grupos políticos cambien de posición política ese es un éxito extraordinario porque yo recuerdo perfectamente aquí cómo la portavoz del partido nacionalista vasco que ya no está aquí y que sí está

defendió con contundencia y claridad

del aforamiento así fue el grupo parlamentario del partido nacionalista en esta cámara defendió en un primer debate con clara contundencia el aforamiento y el éxito de este humilde servidor público

que quizás haya algunos grupos que hayan cambiado de opinión durante los últimos años y este es un éxito de upyd que usted tiene que reconocer

yo no ejerzo de cronista me mojo planteo debates me reitero efectivamente me dice usted que el lehendakari en su momento dio su opinión y que ustedes están esperando a cuáles son las reformas legales que nosotros planteamos ustedes también pueden plantearlas tanto que hablan de reformar

por ejemplo para suprimir el aforamiento porque únicamente hablan de reformar el estatuto para avanzar hacia el nacionalismo

la reforma también puede ir encaminada a suprimir la figura del aforamiento yo lo que quiero saber es que efectivamente ustedes están a acometer todas las reformas legales que sean necesarias para suprimir los aforamientos

no estamos a favor del aforamiento nosotros únicamente décimos o hacemos un resumen de las cosas que han pasado en los últimos años yo quiero saber si el gobierno vasco estaría dispuesto a impulsar todas las reformas legales que sean necesarias para suprimir el aforamiento creo que es un asunto importante

el partido nacionalista vasco en esta cámara como el resto de grupos votó en contra de aquella iniciativa

y además se me acusó de hacer demagogia y de hacer anti política esta es la realidad de los hechos lo cierto es que tenemos en españa nada más y nada menos que

aforados en otros países de nuestro entorno tienen diez dos uno o ninguno en españa

o mejor dicho algunos privilegiados parlamentarios y senadores parlamentarios autonómicos presidentes autonómicos miembros del gobierno

el presidente del tribunal superior de justicia los fiscales de

el defensor del pueblo sus adjuntos los consejeros del tribunal de cuentas del consejo de estado los generales del ejército los almirantes el fiscal togado

guardia civil policía autonómica y hasta la policía local unos aforados al tribunal supremo otros a los tribunales superiores de justicia y otros a las audiencias

son los aforamientos que corresponden a los representantes públicos esto hay que suprimirlo porque es un privilegio y porque rompe la igualdad

de regeneración de la democracia esto es lo que yo propongo esta es mi actividad política tratar de plantear argumentos

encaminar a este gobierno o al gobierno de españa a tomar una serie de medidas evidentemente un solo parlamentario no puede plantear todas las reformas legales que

de abrir ese debate y sobre todo de ganar con argumentos ese debate nosotros vamos a plantear una moción para instar al gobierno vasco y al gobierno de españa

la institución del aforamiento vamos a comprobar si efectivamente algunos de los grupos han cambiado de opinión en los últimos años y esos pasos pueden ir dándose yo creo que sí pero en todo caso diga usted señor lehendakari señor erkoreka

de que lo que usted pretendía con sus iniciativas en relación con el aforamiento

como dejar constancia pública y sobre todo transmitir a los medios de comunicación la imagen de que usted está en contra del aforamiento sí sí porque cuando yo he contrapuesto al cronista con el parlamentario no lo he hecho con el político están retocadas ligeramente mis palabras

el parlamentario está para generar debates pero está también para presentar iniciativas usted tiene una serie de atribuciones que le reconoce el reglamento de la cámara

usted nos dice y yo estoy a favor de la modificación de estas normas de que se supriman estas instituciones que aparecen recogidas en el ordenamiento jurídico

para hacer posible eso usted puede presentar iniciativas de reforma normativa aquí en la cámara y someterlas al debate y consideración de la cámara puede hacerlo sin embargo no lo hace

la idea de que usted está en contra del aforamiento pero en realidad no a actuar firmemente y utilizar todos los mecanismos que tiene a su alcance para trabajar por la supervisión del aforamiento esa es la curiosa

eso es lo que llama la atención por otra parte de su actitud en la cámara que es verdad que es reiterativo

una vez más nos dice que lo que va a plantear en una iniciativa que insta al gobierno central

reformas legislativas o todas las actuaciones que sean necesarias para llevar a cabo esas reformas pero esa es la misma que se metió a la consideración de la cámara la misma que se sometió en junio del año dos mil catorce es decir dos años más tarde viene exactamente con lo mismo

luego me dice que aquí los grupos parlamentarios han ido evolucionando en función de su influencia o de su capacidad de persuasión

de este gobierno vasco en relación con el aforamiento cada vez que hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre él a requerimiento suyo o de terceras personas tanto

sobre estos temas que no lo sé siempre hemos sido claramente críticos con la figura

en ningún momento la hemos defendido y hemos sido partidarios de apoyar los procesos de reflexión

de cara a plantear su reforma su revisión o promover su supresión eso que esta cámara se comprometió hacer en junio del año dos mil catorce usted comprenderá que habiéndose acordado en esta cámara el compromiso de iniciar un proceso de reflexión en torno a esta figura que el gobierno le recuerde ahora que la cámara se comprometió a sí misma a iniciar un proceso de estas características y que ahora le diga que está esperando a que la cámara alcance una conclusión pues tiene su lógica comprenderá que tiene su lógica sobre todo cuando se trata

que tiene que arrancar de esta cámara es esta cámara la que en su caso debería poner en marcha los procedimientos de reforma normativa que pueden desembocar en la supresión

usted sin ir más lejos y sin necesidad del apoyo del concurso del respaldo del gobierno lo puede hacer sin más consideraciones hágalo

active los mecanismos que el reglamento pone a su disposición no se escuda una vez más en ese debate genérico que usted plantea y la influencia que ejerce sobre las opiniones del resto de los grupos parlamentarios está bien

pero ejerza de parlamentario active los mecanismos del reglamento que lo puede hacer

esto es posible y entonces usted podrá comprobar cuál es la actitud del gobierno vasco a este respecto porque una proposición de ley presentada por un grupo parlamentario

no tenga ninguna duda en relación con esa iniciativa que usted presentará que no dudo que lo hará ejerciendo de parlamentario y no de cronista eskerrik asko

el escenario político y queremos quiero por lo menos contribuir a consolidar un escenario y convivencia al que creo que ayudamos contribuimos a crear quienes hemos sido recientemente juzgados en ese sentido creo que la paz y la convivencia democrática para que sean de verdad tienen que ser para todos y para todas y profundamente que eso ya no pueda ser realidad porque sé que faltan muchas demasiadas personas a consecuencia de las diferentes violencias que hemos sufrido y tengo muy claro que a todas esas personas les debemos la memoria el reconocimiento y la reparación y creo

política tiene que servir en la medida de lo posible para tratar de aliviar el sufrimiento que les ha producido que les produce la ausencia de sus seres queridos

lo peor que tuvo aquel escenario político en el que vivimos es que llegamos a deshumanizar al adversario

sus derechos humanos dejaron de ser imprescindibles y así nos deshumanizamos nosotros mismos también creo que precisamente lo que no tiene que volver a suceder nunca más y sobre esa base sobre la base del respeto a los derechos humanos de todas las personas es sobre la que queremos construir un país para todos y para todas nosotros y nosotras

queremos construir un estado vasco porque entendemos un instrumento seguramente el mejor que conocemos para satisfacer las necesidades económicas sociales y culturales de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas

contento estoy satisfecho por toda la solidaridad que he recibido alguna ha sido más explícita otra

todas ellas las agradezco y quisiera esa solidaridad ponerla darla como base

en este mismo parlamento y para ser más explícito creo que es momento de crear una nueva relación política entre el partido nacionalista vasco y eh bildu diferentes por supuesto tenemos planteamientos contrapuestos en muchas cuestiones pero estas dos fuerzas políticas están llamadas a hacer

completamente irresponsable también creo que nos hemos puesto hemos hablado y nos hemos puesto de acuerdo en sanidad educación en vivienda

pero creo que es el momento de llevar esa relación a otro nivel a un nivel más político en el sentido de que lo que está pasando ya en la calle

porque no solo hay que darle cobertura sino también impulsarlo hay que normalizar las relaciones políticas hay que normalizar la política en euskal herria en todos los sentidos en ese sentido antes hablaba que la paz y la convivencia democrática tienen que ser para todos y para todas

para que fuera para todos y para todas también tendrían que estar aquí quienes faltan los presos y las presas vascas solo la paz será verdadera

cuando todos y todas estemos y quisiera pensar que el paso que algunos hemos dado en los juzgados puede servir también para abrir algún día antes que tarde

algunos pensarán que fue una jugada hiper táctica pensando que nosotros no íbamos a entrar y que

con intención de hacer daño a nadie creo que fue una actitud sincera

para intentar el diálogo entre las partes más alejadas de esta cámara

iba a poder ser posible por fin el diálogo político entre todos y todas con eso también me quedo y eso también me lo llevo conmigo me parece que es algo positivo

esanda utzi nahiko nuke ha hablado el señor

de los derechos civiles y políticos en relación a los diferentes escenarios habidos antes y el escenario actual ha hablado de contribuir a consolidar

un escenario de paz y convivencia y yo quiero terminar también esta intervención en su ausencia pero también dedicada a él

y es que a pesar de que en su momento lo rechazaron frontalmente años después ustedes llegaron a

intentaron rescatarlo esta misma legislatura lo han invocado en esta cámara

inexorable poder también en materia de paz y convivencia y se lo digo porque estamos a tiempo de aprovechar oportunidades que están en nuestra mano a tiempo de no dejar pasar

referencia a la deshumanización del adversario como estrategia que se ha seguido al necesario respeto a los derechos

en todo tiempo y uno de los trenes a los que yo me quiero referir es el suelo ético el valor del contenido del suelo ético no es el mismo al principio

el paso del tiempo y la perspectiva de la realidad han puesto de manifiesto la utilidad de ese acuerdo

a leer el texto del suelo ético y comprobarán que su lectura política varía en el contexto del año dos mil doce

de todo lo que ha pasado y de lo que no ha pasado a la luz de lo que está pasando y no está pasando

de sus acuerdos de conformidad en la audiencia nacional y de los cambios sociales que se están produciendo y si lo leen

de la parálisis y el inmovilismo y el texto del suelo ético que dice la paz y la convivencia futura

el reconocimiento del daño causado y de la dignidad de todas las víctimas todas ellas merecedoras del derecho a la verdad

es un principio básico y yo me reafirmo en que estamos a tiempo de evitar que dentro de unos años veamos

como el enésimo tren perdido estamos a tiempo en esta legislatura de alcanzar un acuerdo en la ponencia parlamentaria

nunca es tarde para un consenso que deje establecidas las bases de un proyecto de diálogo y acuerdo multipartito sobre convivencia futura en euskadi

la oportunidad que todavía no se ha perdido planteo ratificar de manera expresa la literalidad y el espíritu del texto citado del suelo ético dejar abierta a nuestra sociedad una esperanza cierta de construcción compartida de país y convivencia arraiz jaunak

y por eso a pesar de que él no esté presente en este momento en el salón de plenos de la cámara pero seguro que me estará escuchando y sino ustedes mismos y mismas les podrán

lo que quiero decirle tal y como tuve ocasión de expresarle ayer personalmente y es que lamento su situación personal comprendo sus reflexiones y quiero reconocer la trascendencia del acuerdo de conformidad que han alcanzado

es positivo asumir la autocrítica aceptar los beneficios penitenciarios individuales y reconocer el daño injusto causado es necesario y es positivo inicia el señor arraiz una nueva etapa

y estoy convencido de que vamos a volver a coincidir en el trabajo por los valores y principios de la normalización de la convivencia en euskadi así lo espero eskerrik asko

quiero mostrarle nuestra disconformidad nuestro enfado y nuestra preocupación por la constante y continua del reglamento de esta cámara nosotros entendemos porque no es nuevo y además entendemos que es una buena práctica que a los parlamentarios que van a dejar de serlo se les permita

auténtica una vergüenza democrática es que el punto cinco perdón el punto siete orden del día en el que se iba a tratar supuestamente sobre la estrategia recentralizadora

esto no es razonable señora presidenta nos parece una vergüenza democrática esta vuelta al ruedo nosotros creemos que el futuro de euskadi

pero con memoria y lo que no puede ser lo que es inaceptable desde un punto de vista democrático es que esta cámara

de juntos por el sí vasco haya asistido a un aplauso a quien la justicia ha condenado por pertenecer a una banda terrorista difícilmente vamos a ser capaces de construir un futuro en esta sociedad de entendimiento y de convivencia

salgan con aplausos quienes han reconocido pertenecer a una banda terrorista una cosa es

y otra cosa es que se nos tome por idiotas y por ahí este grupo parlamentario

y no es la primera vez que sucede le pido rigor en la aplicación del reglamento

de parlamentarios que no se aplauda y que no se enaltezca como héroes
han reconocido pertenecer a una banda terrorista muchas gracias eskerrik asko borja sémper jauna nik

le quería pedir un favor político o hacerle una exigencia más bien

el reglamento del parlamento vasco de manera estricta cosa que lleva rechazando desde el inicio de esta legislatura lo cual me parece absolutamente inaceptable

en ningún caso conflictivo que haya podido darse eso por un lado señora presidenta también le quiero decir que me parece inaceptable que usted haya permitido que

un mitin político y me parece lamentable y esto ya va directamente dirigido

me parece lamentable que ustedes hayan aplaudido a una persona que fue miembro de una banda terrorista que sigue sin pedir perdón

las actividades terroristas de eta esto ciertamente señora presidenta ha vuelto a ser absolutamente lamentable se reitera en el tiempo y usted en lugar de mantener los debates o dirigirlos lo que hace es ponerse a disposición de determinados grupos nacionalistas de esta cámara

una necesidad no solo porque así lo exija la citada orden sino porque además una persona docente debe tener conocimiento de las lenguas al igual que lo debe tener de las nuevas tecnologías es una

por tanto considero sinceramente que no se trata de una discriminación lingüística sino de la necesaria y lógica adaptación a las exigencias de la sociedad actual

discriminación lingüística que no tiene ningún sentido ya existen líneas para obtener el título de educación infantil y primaria en euskera por lo tanto qué sentido tiene que oferten una supuesta titulación en castellano obligan a esos estudiantes a tener unos conocimientos mínimos en euskera a superar unas asignaturas con un determinado número de créditos en euskera si efectivamente esas personas que están estudiando ahí puede que después no vayan a dar clases en euskadi por lo tanto

el euskera entendemos por lo tanto que estamos ante un caso de discriminación lingüística y de imposición lingüística el único sentido es la de discriminar

no hay ninguna otra justificación no quieren maestros que estudien en castellano no quieren personas libres que elijan libremente en qué lengua quieren estudiar

excluyentes es el sectarismo del nacionalismo de toda la vida y ante ese sectarismo yo

y la universalidad libertad y universalidad

pueda estudiar libremente en el idioma que considere para a partir de ahí buscarse su propio futuro profesional y vital aunque ya entiendo que el nacionalismo es contrario a cualquier tipo de libertad en última instancia y desde luego

lingüística ustedes que tanto defienden el derecho de los euskaldunes a poder relacionarse en euskera y a poder desarrollar su vida en esa lengua cosa que evidentemente nosotros compartimos

de los castellano hablantes o de justificarla por altas razones

para poder estudiar en su lengua materna no es excusa que los futuros maestros que vayan a trabajar en euskadi van a tener que dar clases en euskera quiénes son ustedes para decidir esto muchos de ellos darán clases fuera del país vasco y por lo tanto no necesitaran el euskera hay que darles también la posibilidad de que ellos pueden estudiar perfectamente en castellano

de las personas es en nuestra opinión una actitud absolutamente antidemocrática anclada en el pasado que no tiene ningún tipo de justificación muestro mi solidaridad con todos esos alumnos de magisterio

y mi apoyo a la demanda que han presentado ante la upv

para poder estudiar en su lengua mi solidaridad también con todos los empleados públicos que se encuentran con las mismas trabas que estos estudiantes

a una plaza por no saber euskera nuestra solidaridad con todos los que de una

perjudicados discriminados y excluidos por no saber euskera

de este gobierno señora consejera antes que cualquier cosa

señor maneiro recogiendo sus últimas palabras

sus estudios y dónde han estudiado ellos sabían perfectamente cuál era el plan de estudios como se lo he dicho antes y cuáles son las lenguas por lo tanto ellos han tomado la decisión no es una decisión impuesta jaurlaritza honek ez du uste

al inicio de la carrera se realiza una evaluación a fin de ofrecer a cada alumno y alumna un diagnóstico personalizado a cerca de su competencia lingüística

acerca de la forma de mejorarla y paralelamente se organiza un sistema intensivo de formación que ofrezca la posibilidad de dar un impulso significativo a nivel de competencia comunicativa en euskara del alumnado

presidenta hago esta pregunta para que el gobierno me aclare cómo está la situación en relación al cumplimiento de la ley de adicciones en san mamés seguramente el consejero responderá y podrá aclararnos si efectivamente ahí también

vigente no es otro mi propósito incluso les puedo recordar que yo mismo me abstuve en relación a la modificación de esa ley de adiciones por diferentes causas pero dicho esto entiendo que una ley una vez que entra en vigor pues tiene que al conjunto de los ciudadanos y no puede haber ningún tipo de exclusión y según las noticias que hemos conocido lo cierto es que en los palcos

antes y después de los partidos oficiales de competición es decir se estaría vulnerando la legalidad vigente

lo reconoció queríamos saber por lo tanto si esto sigue siendo así y si se ha tomado alguna medida contra el athletic por la clara vulneración de la ley de adicciones habría producido en los últimos partidos de fútbol ya digo que tampoco tengo intención o especial intención o deseo de que se sancione

en fin la legalidad vigente pueda cumplirse en todos los ámbitos y sea aplicable para todos de tal forma

ciudadanos de primera frente a ciudadanos de segunda cómo está la situación se cumple ya la ley también en san mamés señor consejero

qué pasos va a dar en caso de que no se esté cumpliendo etcétera estas son las preguntas que yo quería hacerle gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

que el nombre de la ley no es ley de adicciones que fue el propuesto por el gobierno sino que el nombre de la ley como muchos aspectos de la ley que usted conoce fue modificado y aprobado por este parlamento y el nombre es ley integral de adicciones

en segundo lugar en relación a su pregunta sobre las medidas que se han tomado o que se van a tomar

que el objetivo de la ley el anteproyecto que mandamos nosotros a esta cámara y entiendo que el que salió de esta cámara el objetivo de la ley no es punitivo esto es no pretende actuar contra nadie a pesar de ello se han enviado cartas a las diferentes entidades deportivas tanto

como municipales recordando los aspectos de la ley que les afectan directamente eusko jaurlaritzako osasun sailak

badakizula dicho esto como conoce en el último pleno de control

a dos preguntas en el mismo sentido repetiré lo que dije entonces la prohibición de suministro y venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones en las que se celebren

es igual para todos y todas las asistentes a la celebración del evento deportivo con independencia de cuál sea la ubicación de su localidad y esto no va en contra de nadie es para todos kirol lehiaketak egiten diren instalazioetan alkoholdun edariak banatzeko

el parlamento vasco ha aprobado esta nueva ley como cualquier ley para que se cumpla eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias señor consejero el título de la ley ya me lo conozco gracias y el contenido también nosotros no apoyamos la modificación entiendo que cuando una ley se aprueba tiene que aplicarse y entonces yo le pregunto si efectivamente también en san mamés se está respetando el cumplimiento estricto de esta ley esa es la pregunta y en el caso de que no se haya cumplido como así parece si se va a imponer algún tipo de sanción usted señala que el objetivo

actuar y por lo tanto las dos preguntas son claras en san mamés se está vulnerando la legalidad vigente y en concreto la ley de adicciones y en el caso de que esto haya sido así o siga siendo así el gobierno va hacer algo y en concreto le pregunto qué es lo que va hacer o si va a sancionar

esta es la pregunta ya sé que las leyes lo que tienen como objetivo es que se cumplan que todo el mundo las cumpla y que no haya que

hay en este caso un club de fútbol que no está cumpliendo la legalidad vigente entiendo yo que el gobierno tiene que hacer algo y todo esto ya digo en defensa sobre todo de la igualdad ciudadana porque entiendo que hay miles de ciudadanos vascos que cumplen leyes

como consecuencia de ello y en el caso de que haya quien no cumpla esas leyes reciben sanciones y castigos espero que esto sea así

la ley tiene que ser igual para todos y por lo tanto esas son las preguntas que yo le hago si efectivamente se cumple ya la ley en san mamés en concreto en los palcos

maneiro jauna yo creo que no tiene usted ninguna duda de lo que va hacer el gobierno vasco y desde luego lo que va hacer el departamento de salud creo que le he contestado

lo vuelvo a repetir está usted en su derecho de interesarse por este tema pero también conocerá que antes de la aplicación de la ley integral

el consumo de alcohol en las instalaciones deportivas ya estaba expresamente prohibido por la ley del deporte del país vasco en su artículo ciento tres y por la ley

contra la violencia en racismo la xenofobia y la intoleranciaen el deporte en su artículo cuatro

se cumpla el objetivo de la ley es proteger la salud de todas las personas velando en especial por la salud de los menores y de los colectivos más vulnerables y dije también en el último pleno de control que en el inicio de andadura de esta nueva ley

dado que afecta a usos y costumbres arraigados

con la ley antitabaco en el año dos mil once y afortunadamente la situación hoy es francamente buena cumpliendo los objetivos de la ley

para buscar un castigo punitivo sino vamos a buscar el objetivo de la ley y en eso estamos eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

lehendakari consejeros señora consejera le interpelo en nombre del grupo popular referente a la estrategia para el impulso de la producción y comercialización

presentada por usted misma el dos de mayo es decir hace dieciocho días podríamos decir en los últimos minutos de prórroga del partido porque como es público

pero aun así el grupo popular considera que se necesita una estrategia para el sector de carne en euskadi también consideramos desde el grupo popular que esta estrategia era urgente hace bastante tiempo aun así

ante este anuncio y pensando que más vale tarde que nunca intentamos mirarla con objetividad y ver qué propone lo primero que se ve es la foto la foto gobierno vasco y tres diputaciones con sus cargos de dirección es decir el toque de campaña del euskadi buru batzar podríamos decir está hazi en la foto y efectivamente está en la foto pero

haya aportado algo a este documento que es la estrategia que tenemos

porque francamente conociendo a los profesiones que están en hazi en el sector de carne no los veo haciendo esta estrategia

es otro también están los sindicatos el sector y un matadero todos los de la foto tienen partida específica en los presupuestos del gobierno vasco esto es un dato

pero vamos avanzando cuál es el objetivo de la estrategia el objetivo de la estrategia es avanzar en la competitividad del sector primario de euskadi vinculada a una industria alimentaria fuerte y a una comercialización sostenible

en la competitividad del sector de la carne de vacuno cuando estamos ante un sector que como en la propia estrategia se dice que es de baja productividad que existe un déficit estructural que el precio está estancado no lo dice la estrategia pero es una realidad

en alza el volumen de impagos a los productores que existen cada vez más prácticas

si no es un sector competitivo como la propia

qué significa avanzar en la competitividad significa que ignoramos a gran parte del sector ganadero y apostamos por como dice el primer punto

que esta estrategia marca incentivar la actividad de los cebaderos eso es

otra gran estrategia otra gran actuación ayudas de inversión que fomenten la producción de carne

medidas para paliar la falta de competitividad de cebar terneros sí es una estrategia pero es una estrategia de medidas de apoyo a la producción

en los últimos diez años en la comunidad autónoma vasca constituye una debilidad después del cierre de vitoria bilbao y durango decir que el

en estos últimos diez años se han cerrado bilbao y durango no voy a hablar de vitoria y bilbao porque ellos coinciden algún elemento negativo que coincide y que siempre gana es de los que siempre

si hablamos de durango tengo que decir que fue un modelo de gestión de éxito contra viento y marea y a pesar de todo fue exitoso y ahí están los datos trabajando con el modelo de producción tradicional de carne de euskadi pagando precios competitivos al productor

haciendo promoción de la carne de producto de procedencia local este modelo de éxito lo cerró quien no podía soportar no saber hacerlo

que suscita es dónde están los otros cinco mataderos de la comunidad autónoma vasca por qué no han sido ni consultados ni informados señora consejera

que van a crear un grupo de trabajo para analizar la problemática de las infraestructuras de sacrificio si solo han consultado a un matadero supongo que este es el problema de un matadero esta estrategia es para solucionar el problema de un matadero señora consejera

que hace unos meses le devolvieron un camión frigorífico de carne con destino holanda que fue decomisado en origen porque la carne

irregularidades y que seguramente esas denuncias estén en un cajón señora consejera

dice que la carne local se vende en carnicerías y que estas están en periodo de ajuste además el consumo de carne es decreciente

pero proponen crear una marca nueva hacer evolucionar la marca ampliar el número de carnicerías comprometidas con la marca

vascos sin tener en cuenta cuál es la demanda

valora para nada y para esto o tenemos cuál es la demanda del consumidor o contratamos a un mago para que haga viable

señora consejera esta estrategia es un proyecto en contra del sector el sector de carne tradicional de euskadi

los ganaderos están indignados los carniceros están indignados los mataderos

esta estrategia es un proyecto para servir a la gran superficie

y sacrificada en un matadero concreto señora consejera esta estrategia consideramos desde el grupo popular que es una competencia desleal al sector tradicional de carne de vacuno de euskadi el sector tradicional el pequeño que tiene que existir que es imprescindible señora consejera señora consejera por qué no se ha hablado con el sector de carniceros por qué no se ha hablado con los productores

no se ha hablado señora consejera no conocen

cuenta aquí señora consejera no se puede hacer estrategias de laboratorio hay que hacer estrategias pensando en la realidad

porque cumple unas funciones imprescindibles que si no las hace el sector de carne no va a haber quién las haga señora consejera el sector de la carne se han acordado de él al final de la legislatura

solo pensando en algún proyecto exclusivo no pensando en el sector tradicional y el sector tradicional le repito

el día dos concretamente presentamos esta estrategia las bases principales de la estrategia para impulsar la producción y la comercialización de la carne de vacuno en euskadi un trabajo

durante mucho tiempo y que hemos conseguido poner en marcha ahora acordar ahora estrecho trabajo entre el gobierno vasco las diputaciones forales las organizaciones sectoriales tales como harakai urkaiko y gitxegi los sindicatos enba

y los propios productores del sector de la carne que para tener en contra e indignados como usted dice pues están bastante de acuerdo

es en la búsqueda de ese acuerdo pero no lo digo yo el pasado día

tuvo la ocasión el lehendakari no está en estos momentos pero tuvo la ocasión de conocer de primera mano a algunos productores que estaban por allí y que desde luego si algo dijeron es que esta estrategia hacía falta y que había que ponerla en marcha para no conocerla y para estar en contra

esta estrategia tiene como objetivo revitalizar y reforzar toda la cadena de valor en este sector que consideramos que tiene un papel importante

como una aportación a la economía de euskadi esta iniciativa se enmarca dentro de la política que venimos desarrollando en la presente legislatura vinculada

a su fortalecimiento y crecimiento decía usted que desde el punto de vista de diagnóstico

sin embargo es algo que se ha hecho no solo desde el punto de vista del sector sino de la demanda de todos aquellos que acudimos a diferentes establecimientos

gestionan el ochenta y cinco por ciento de lo que es el territorio de la comunidad autónoma como usted bien sabe en todo lo que es conservación del medioambiente tratamiento del paisaje

envergadura pero sostienen este territorio y tenemos que considerar que desde hace dos años estamos asistiendo a un fenómeno en lo que se refiere a la al posicionamiento del producto local

las estrategias de priorización que estamos realizando en la diferenciación de los canales de distribución y analizando dónde tiene su origen todo esto podemos observar que hay un aumento de la sensibilidad de la sociedad para con el producto local para cómo

si es sostenible económicamente pero también medioambientalmente y observamos además que la situación del vacuno de carne

el consumidor valora positivamente el origen local de la carne de vacuno y está dispuesta a pagar un poquito más y consumir carne que ha crecido aquí

por cierto que ha colaborado activamente como no podía ser de otra manera la producción local además es insuficiente para cubrir la demanda que se produce en estos momentos

y además a la baja productividad de las explotaciones existentes en este momento el precio de la venta de ganado está estancado y el margen es negativo en estos momentos al margen de las subvenciones que estamos poniendo sobre la mesa la carne local se vende principalmente en carnicerías y estos establecimientos necesitan actualizarse la oportunidad de la venta a través de supermercados e hipermercados

muy concreta que se pueda realizar sobre el producto local y los precios que el consumidor está dispuesto a abonar permiten obtener unos márgenes

un análisis mucho más profundo que lo que le he leído desde luego y para corregir las debilidades detectadas la fundación es quién lidera la estrategia de acuerdo con el gobierno sí diputaciones forales también y el propio sector empezando por las carnicerías y acabando por los productores

con todos ellos evidentemente cuando una estrategia cualquiera se pone en marcha el cien por ciento de los productores y el cien por ciento de los distribuidores no estarán de acuerdo como probablemente cuando se aprueba algo en esta cámara suele ser

pero eso no significa que no haya un consenso suficientemente importante como le he leído

dígame usted en qué otra estrategia pues en esta desde luego lo están y están dispuestos a hacer una apuesta porque esto sea una realidad por fortalecer además la marca euskal okela con el objetivo de alcanzar de tener una herramienta eficaz en la defensa del sector productor y comercializador de la carne local de la carne vasca

porque segmenta el mercado tradicional la gran distribución

de cuarta y quinta gama es decir aquellas que aportan mayorvalor y ataca a todas y cada uno de esos aspectos pero volviendo de alguna forma a lo que usted decía

desde luego desarrollar políticas concretas son cuatro por una parte incentivar la producción de carne de vacuno incluyendo

la creación de un grupo de trabajo para analizar la gestión de las infraestructuras de sacrificio sí los mataderos algunos de los cuales son municipales y otros privados pero que todos

en tercer lugar estaría la revisión del esquema de canales en matadero y la porción que va al consumidor en la sala de despiece y por último

con la puesta en marcha de un co branding del canal

ahondo más en cada una de ellas en la primera es decir en aquella

de alguna forma se aboga por adoptar medidas que permitan desestacionalizar la producción para por una parte paliar las pérdidas y compensar la falta de competitividad que existen en muchas de nuestras pequeñas explotaciones y que nos permita

ajustar los ciclos productivos a la demanda y la demanda es exactamente igual o muy parecida a lo largo de todo el año el apoyo decidido además a la mejora genética en las explotaciones con el objetivo de que los resultados que se están obteniendo en las explotaciones mejore

en los centros de testaje que ya tenemos que se adopten medidas dentro del plan de desarrollo rural muy concretas de apoyo a la producción de carne y que la fomenten que se adopten medidas como usted decía para financiar el circulante evidentemente cómo no lo vamos a hacer con personas que están haciendo una apuesta por continuar en esas producciones en esas explotaciones que hoy en día no son operativas y muchos menos sostenibles económicamente

en cuanto al aspecto de mataderos la segunda de las líneas de acción hemos observado que la evolución de los mataderos en los últimos diez años ha sido evidentemente caracterizada por muchos cierres como usted decía primero vitoria después bilbao

y constituyen una debilidad importante en el sector y hay que analizar qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer pero evidentemente no solo como gobierno sino con todos los implicados en cuanto a los sistemas de certificación se plantea la modificación

basado en el pesaje sobre todo y tratar de realizarlo de una forma mucho más estricta a través de un análisis genético que ya está desarrollado y que lo podemos implementar

que garanticen la trazabilidad de la carne local y que nos permita garantizar que realmente se está produciendo venta de carne local y por último el nuevo proyecto de valor

las carnicerías tradicionales necesitan una modernización evidentemente y necesitan que les ayudemos y que la imagen de marca de alguna forma les haga sentirse mucho más cómodos y muchos más orgullosos de lo que están haciendo a ellos y a las personas que vamos a comprarla de todas formas
en el segundo turno ahondaré en este aspecto eskerrik asko eskerrik asko

si solo han participado un matadero en esta estrategia cómo sabe cuál es la evolución de los mataderos

no la conoce porque no se les ha consultado ni lo que piensan ni cuál es su proyección de futuro ni cuál es su estrategia de futuro no han consultado con el resto

pero es que esta estrategia está hecha exclusivamente para un matadero para un matadero que no sabe cómo

porque ya le he dicho antes que ha habido modelos de matadero que han sido exitosos

no lo hace no le da el resultado positivo a pesar

nominativa todos los años y es incapaz

para que un matadero tenga éxito porque ya está demostrado que no sabe hacerlo

señora consejera por lo tanto le agradecería que mire a todo el sector no a salvar a un matadero y ahogar al resto que es a lo que siempre ha querido

tan antiguo que es del siglo pasado por lo tanto señora consejera dejemos que funcione el sector primario que colaboremos pero que no destruyamos

y usted sabe que esta estrategia anula el sector tradicional porque no es una estrategia para ellos no es una estrategia para el pequeño porque el pequeño tiene demasiada autonomía y me incomoda no me obedece

eso es lo que quieren pero no es así y mira que lo van intentando y fracasan una vez y fracasan otra vez y ahora es la tercera vez y así seguimos

ganadero una vez más y otra vez una estrategia del sector de la carne habla de hazi que ha participado mire yo conozco a los técnicos de hazi hace bastantes años

hace bastantes años y sé cuál es su modelo sé lo que opinan

en el texto porque eso no es habitual en el sector de la calle eso no es habitual quién ha hecho ese texto

no no es habitual por lo tanto señora consejera ese texto destila muchas cosas que demuestran

realizada en un laboratorio que lo mismo hace una estrategia para la carne que para el coche o sea así de claro un corta y pega

para hacer un modelo para una estrategia concreta

los cebaderos que me producen me traen a matar la carne y yo lo pongo en la línea de la gran superficie eso es la estrategia no están pensando en el pequeño productor

y decía es que fíjese se han puesto en la foto pero

pero es que viven del presupuesto del gobierno vasco subsisten por el presupuesto del gobierno vasco y claro

claro si esto está todo perfectamente ligado esto es muy antiguo señora consejera pero muy antiguo la verdad es que han vuelto ustedes a prácticas que ya pensábamos estaban olvidadas pero ustedes siguen con ese

se recrean en lo antiguo en lo clásico no señora consejera la verdad es que después

de tres años y medio en el departamento con un sector de la carne

y que ese documento lo vendan como un éxito es muy triste señora consejera muy triste

es que como siempre se ha hecho así y siempre lo han hecho así las personas que trabajan ahí

de modernizarse de evolucionar de hacer propuestas diferentes y trabajar de forma diferente porque como siempre se ha hecho así no de verdad lo triste es eso lo antiguo es eso vamos a mirar al frente y de verdad todo el sector

que se suelen poner de acuerdo en pocas ocasiones y en este caso se han puesto de acuerdo para poner en marcha esta estrategia con cuatro líneas concretas con cuatro líneas concretas de actuación

hacerse sumisos al gobierno vasco por favor ya somos un poco mayores

no los menospreciemos para estructurar el sector y hacerlo competitivo igual que se hizo en su momento en la leche y ha salido muy bien en este momento la carne lo necesita lo demanda y se ha puesto de acuerdo para hacerlo usted me habla solamente de mataderos y el resto de cosas

que el sector ha pedido constituir una mesa específica que lo analice lo han pedido ellos y evidentemente lo analizaremos pero usted no me va a decir que porque en un determinado momento alguien consulta para una cosa puntual sabe perfectamente lo que ocurre en ese sector o al contrario tenemos una fundación hazi a la que usted por lo visto conoce a todos y cada uno

a todos y cada uno y sabe usted cómo piensan perfectamente son técnicos desde luego cualificados que saben hacer análisis y que saben lo que está pasando en el sector

y no es ni de laboratorio ni cosa por el estilo parece que a lo que usted le duele de verdad

un sector que está constituido por esas personas productoras de diversas características con explotaciones más pequeñas

que quiere poner en valor la comercialización de esa carne que quiere desestacionalizar la situación que quiere que las carnicerías también pequeñas las tradicionales tengan producto todo el año que los que vamos a comprar compremos carne local y eso se hace a través de una estrategia de estas características que nos ha costado mucho

a todo el sector porque evidentemente para poner de acuerdo a todo el sector hay que tener en cuenta

y esto no sale de la nada nace del acuerdo absoluto de esas personas de todas esas personas con intereses bien diferentes porque el productor no es igual que el comercializador

y a todos se les atiende y se tiene en cuenta absolutamente toda la cadena de valor y de verdad lo que me produce tristeza es que usted se moleste

triste en este momento eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

buenos días muchas gracias señora presidenta consejera consejeros señorías bien después del espectáculo de esta mañana da la sensación de esterilidad tratar de arreglar los problemas del país

de fracasos empresariales tipo hiriko de quiebras fraudulentas

de dinero público perdido de las formas de recuperar el daño causado

concedido etcétera y bien yo sé que tiene que ser duro que las cosas que uno concibe que uno trata de organizar y sobre todo las cosas

sé que es duro que cuando se derrumban y fracasan hacen daño y no se sabe muy bien cómo reaccionar y puede parecer que eso le pase al pnv y al gobierno vasco en relación con lo que

y que se vinieron abajo pero hay que decir una cosa señora tapia esa decepción del partido nacionalista vasco no puede ser de la sociedad vasca y por ello hay que actuar esa decepción del partido nacionalista vasco con sus proyectos

no puede quedarse sin respuesta institucional real

con lo exigible la fiscalía de vitoria acaba de pedir ante el juzgado mercantil se declare fraudulenta la quiebra de afypaida

actividades industriales y deportivas de automoción promotora como todo el mundo sabe

sobre la calificación del concurso culpable están ahí no nos vamos a referir a ellas nosotros queremos que con el fin de recuperar el dinero público

ya sabemos las cantidades el fiscal pide que se tomen medidas oportunas solicita además

etcétera la devolución de todo el dinero concedido

lógico que el gobierno vasco siga de cerca

y que responda a las recomendaciones que se han realizado desde diferentes ámbitos y que exigían actuaciones para recuperar el dinero perdido todo el dinero perdido la totalidad del dinero perdido recibido y mal gestionado

de ese proyecto empresarial fallido fracasado tenemos que recordar las recomendaciones al gobierno

en este parlamento fueron claras y concluyentes la instancia del parlamento vasco era instar al gobierno vasco a que formalice la petición de devolución de las ayudas

estaba claro se hablaba de las ayudas y subvenciones concedidas a afypaida que fueron ayudas y subvenciones que fracasaron que emplearon también tenemos que referirnos como cuestión de referencia al informe de fiscalización de enero de dos mil dieciséis donde el tribunal de cuentas hizo un análisis de lo concedido también desde la administración vasca

y en el análisis está muy claro lo que dijo el tribunal de cuentas del estado en relación con los apoyos procedentes de la comunidad autónoma del país vasco

donde analiza las subvenciones concedidas por la administración de la comunidad autónoma vasca y sus sociedades mercantiles dependientes entre dos mil diez y dos mil doce al consorcio liderado por afypaida

del programa autonómico etorgai de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental la evaluación de la propuesta presentada por el consorcio

significativa la concesión de la ayuda y que supera el porcentaje de subvención máxima previsto

orden reguladora dice el tribunal de cuentas en relación con la documentación justificativa de la subvención cabe hacer extensivas las deficiencias señaladas

al analizar las subvenciones recibidas por epsilon euskadi scincuenta de la iniciativa

tal y como posibilitaba la orden reguladora además los gastos de personal se basó en declaraciones de los propios beneficiarios sin que se acreditase

sin que conste actuación del órgano gestor al respecto sigue

abandonaron el mismo siete de sus integrantes con una participación en el presupuesto del cuarenta y cinco por ciento pese a esta circunstancia la propuesta del órgano evaluador fue favorable lo cual no se considera adecuadamente fundamentado en particular se incumplió el artículo cuatro punto seis de la orden de seis de agosto de dos mil ocho

tendría en especial consideración los proyectos que se desarrollan por consorcios empresariales equilibrados

sobre la solvencia económica de las entidades participantes para ejecutar los proyectos continúa

procedió a la constitución de las garantías exigibles de la documentación que consta en el expediente al menos gastos por doscientos cuatro

no aparecen debidamente justificados en la convocatoria de dos mil once de las ayudas etorgai afypaida no constituyó las garantías recogidas en el artículo tres punto dos del decreto seiscientos noventa y ocho barra mil novecientos noventa y uno de

euros no estaban adecuadamente justificados seguimos

estuviera al corriente de sus obligaciones tributarias antes del abono del primer pago de la anualidad dos mil once por otro lado ante la ausencia de acreditación del incumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social sigue en la convocatoria de dos mil doce en las ayudas a etorgai ni afypaida

scincuenta constituyeron las garantías recogidas en el artículo tres punto dos del decreto

no consta una más la presentación de justificación del cumplimiento global del proyecto exigible sobre la base reguladora con carácter previo al último

euros no serían subvencionables sigue

cada una de ellas por subvenciones de acompañamiento del programa ekintzaile sin que

que el proyecto hiriko cumpliera las condiciones necesarias para obtener ayudas establecidas

por otra parte los expedientes no cumplían toda la documentación justificativa señalada en el acuerdo anterior o bien no lo hacían con el detalle necesario adicionalmente gastos de viaje por importe

su relación con el proyecto además gastos por importe de treinta y ocho mil euros realizado dentro del periodo otorgado

de apoyo previsto en el caso de haber considerado el inicio del plazo para incurrir en este tipo de gastos la fecha en el que el conjunto del proyecto se dio a conocer a la administración vasca

señora consejera un cúmulo de irregularidades desde el principio a estas hay que sumar todas las demás lógicamente esta es la que detalla

o de análisis de las subvenciones pero muchas más en relación con la solidez ya lo decían las conclusiones también de determinados análisis lo dicen otros escritos oficiales en relación con procesos abiertos

en este caso presunto concurso culpable hay una necesidad de actuación de las administraciones de todas en este caso tenemos que hablar parece que están actuando otras administraciones

en el saqueo público de recursos pero ustedes tienen responsabilidad tienen responsabilidad

actuar y en ver la responsabilidad de los administradores identificarla y desde luego esa responsabilidad hace que necesitemos saber

cómo se va a conseguir y qué pasos se están dando y qué pasa ante la justicia que tiene procedimientos abiertos y en relación con la devolución

lo que presuntamente es una quiebra culpable pero en cualquier caso ha sido un fracaso empresarial fundamentado en actuaciones públicas

que le toca al gobierno vasco ya hemos visto algunas actuaciones de otros gobiernos pero la parte del gobierno vasco cuál es el criterio o el propósito en relación

eskerrik asko presidente andrea señor barrio continuamos hablando

a pesar de que las hemos explicado mil veces y gracias por leernos todo el informe del tribunal de cuentas que ya lo tenemos y lo hemos leído pero bueno se lo agradezco en cualquier caso

el proyecto hiriko concretamente es un proyecto no empresarial es un proyecto como usted bien sabe de desarrollo de más primero con unas condiciones muy diferentes

bien sabe porque están definidos de una forma que los define europa y los aplicamos nosotros estrictamente dicho esto

detalladamente las subvenciones de los años dos mil diez

cuáles fueron los análisis de esa evaluación cómo se ejecutaron las ayudas en qué porcentaje se ejecutaron respecto de lo inicialmente previsto en concesión

eso está detallado y usted lo sabe perfectamente y en la comisión de investigación también se detalló por tanto no voy a reiterarlo pero sí recordarlo me dice usted que nos hace especialmente daño yo creo que a quien le hace igual especialmente es a quien se fotografió con aquel coche y se mostró

porque era un proyecto de investigación que podía tener visos de éxito un proyecto de investigación que se desarrolló que es cierto que falló en cuanto que su traslación

no ha tenido desde luego el éxito esperado y eso es cierto pero el proyecto de inicial y por eso obtuvo las ayudas etorgai que obtuvo

también como conclusiones de la comisión de investigación a las que usted hacía referencia se establecían una serie de actuaciones que teníamos que llevar a cabo como gobierno y que desde luego hemos llevado a cabo y las repito creo que hace quince días también las comenté

reitero de nuevo allá donde

en el denominado órgano para la evaluación de las solicitudes donde se determinan

actuar ante esas solicitudes desde el luego lo que hemos hecho es mejorar esa unidad de tal manera que los trabajos que se realizan de estudio y evaluación de las propuestas

dotadas con más personas y se realizan de una forma más estricta de acuerdo con las últimas normativas que llegan desde europa o las últimas recomendaciones que no normativas por tanto se ha mejorado el procedimiento de evaluación se ha reforzado con personas y con una labor de monitorización

en el caso de que sean de aplicación tecnológica y de aplicación industrial dándole al sistema un carácter

de acuerdo también con recomendaciones europeas un sistema integrado de monitorización y evaluación también lo dije aquí y lo reitero un sistema que permite evaluar de una forma estricta en el momento de solicitud del proyecto que monitoriza el seguimiento de las distintas fases del proyecto que evalúa

y que al cabo de tres años es decir una evaluación

evalúa cuales han sido los resultados tanto en creación de empleo como en creación de productos o procesos de valor añadido y que nos permite por una parte tener una radiografía completa de lo que se ha realizado y por otra parte poder mejorar tanto la evaluación como los propios programas en sí mismos por tanto es un sistema realmente novedoso y así se ha reconocido además hemos modificado como usted bien sabe el decreto de reordenación de la red vasca de ciencia tecnología e innovación para que también sea más moderna la forma en la que se valúa el cumplimiento de todas tareas que se les encomienda y se ha modificado

para que se adapten a las recomendaciones del sistema de monitorización y evaluación y el seguimiento sea aún más estricto

y más objetivo eso en lo que a las recomendaciones de la comisión de investigación hace referencia

a parte qué están haciendo en cuanto a la recuperación de ayudas en primer lugar señalar insisto que ya en el año dos mil doce ante un cierto incumplimiento de lo que debía ser esas ayudas se solicitó ya una devolución concreta

pero desde el punto de vista de nuestra personación en diferentes ámbitos le voy a decir que la dirección de lo contencioso del gobierno vasco

en primer lugar en las diligencias previas ante el juzgado de instrucción número tres de vitoria gasteiz la jurisdicción de lo penal atendiendo a una moción aprobada en este mismo parlamento

atendiendo a lo que dice esa moción el consejo de gobierno de doce de mayo de dos mil quince

en la citada causa en cumplimento de dicho acuerdo el acuerdo del consejo de gobierno el letrado de los servicios jurídicos centrales

al juzgado mencionado la personación en calidad de perjudicada de la administración general de la comunidad autónoma en las diligencias previas que acababa de abrir

el gobierno vasco ha estado presente se ha personado y ha tomado parte en las distintas diligencias que se han realizado

que en la actualidad siguen su curso en segundo lugar estamos también personados en el concurso de acreedores en el juzgado de lo mercantil número uno

civil y mercantil siguiendo la tramitación habitual se transmitió a la dirección de patrimonio y contratación

que existía el concurso de acreedores abierto ante el juzgado de lo mercantil número uno de gasteiz en relación con la asociación afypaida y conjuntamente con dicha comunicación además se procedió a dar traslado de los créditos que según el servicio de contabilidad de la administración general de la comunidad autónoma

en ese procedimiento el letrado de los servicios jurídicos centrales se personó en la causa y en fecha veintiuno de abril de dos mil quince comunicó al administrador concursal

los que le he mencionado anteriormente que se habían solicitado devolución

y que han encontrado reflejo además en la lista de acreedores aprobada por dicho administrador concursal el trece de junio del pasado año

se da por aprobado el plan de liquidación que ha presentado el administrador concursal y se abre plazo para en su caso calificar como culpable tal como usted decía dicho concurso

el montante económico de los créditos que hemos presentado y siguiendo nuestro proceder habitual la administración de la comunidad autónoma del país vasco nunca

nosotros no lo hemos solicitado insisto atendiendo al proceder habitual de la comunidad los servicios jurídicos así lo consideran

no consideramos que sea suficiente como para hacer la solicitud de concurso culpable de todas maneras observaremos qué es lo que ocurre y evidentemente atenderemos todo

por una serie de actuaciones que ellos consideran importantes y estaremos allí personados y analizaremos todo lo que se diga

gracias presidenta gracias señora tapia

todo el mundo sabe que es un proyecto empresarial y que se vendía como proyecto empresarial y que las calificaciones actuales ante los jueces está figura como proyecto empresarial más allá de las consideraciones de investigación y desarrollo e innovación que podría tener claro

de los que se iba a nutrir pero era un proyecto empresarial para confección para

construcción de coches eléctricos era un proyecto empresarial y en ese sentido ha sido ese fracaso empresarial

ustedes qué van a hacer de verdad en los procedimientos judiciales qué van a reclamar a los promotores de hiriko

de cientos de miles de euros que ese han perdido qué van a hacer es decir discrepan

de la administración central que también fue quien concedió

nacionalista vasco discrepan ustedes de los alegatos de las alegaciones del abogado del estado del

y con las responsabilidades y con la quiebra fraudulenta que parece alucinante nunca se ha pedido quiebra fraudulenta no tenemos costumbre pues algún día habrá que hacerlo

es decir no hay costumbre en los servicios jurídicos de la casa

jurídico el que no hay costumbre o sea no sé señora consejera eso lo tiene que fundamentar mucho mejor

cómo valora usted esos viajes irregulares mal fundamentados esas compras inútiles que se realizaban esos sueldos

con empresas como denokinn que no ha justificado nada de lo que hacía no merece eso una presencia activa

no merece una actitud de verdad de conseguir

de lo que ha supuesto un fracaso en relación con las ayudas que se concedieron

está pendiente de que se reclamen y de que se consigan y además es que no estamos en un especie de bueno se está acabando el proceso se está acabando el caso hiriko

estamos trabajando para que se aclare de verdad lo que ha pasado y que se devuelvan los dineros que se han entregado mal

hay que actuar con claridad y la administración lo tiene que hacer y hemos visto en la relación

trabajado por el tribunal de cuentas es que no había justificaciones es que

en los no justificantes las malas justificaciones

investigaciones judiciales ligadas a las empresas que han participado en el caso hiriko

conociendo estos días la existencia de otras presuntas irregularidades que afectan a otras instituciones como la diputación foral de álava en relaciones con empresas íntimamente ligadas al proyecto hiriko como era denokinn bueno pues lo estamos conociendo pues necesitamos una actitud señora tapia mucho más activa y desde luego

están capacitados para eso y mucho más es decir no para quedarse en la tradición jurídica en relación con los procesos que se instruyen y no para pedir

de devolución cuando lo que entregó el gobierno vasco son cientos de miles de euros y además antes y lo ha hecho muy bien el señor erkoreka a una

del señor pastor ha dicho en relación con un caso también que está en los tribunales y que pronto tendrá su juicio que el quebranto público

su actuación como gobierno vasco pues eso señora tapia es lo que

eskerrik asko presidente andrea bueno empezando por el principio señor barrio yo no discrepo con el abogado del estado

nosotros como gobierno de la comunidad autónoma del país vasco desde la unidad

se evaluó todos los años e insisto no voy a reiterar

nosotros sostenemos que las evaluaciones realizadas en el año dos mil diez

en ese caso lo que se decía que se iba a investigar lo que se investigó y los resultados que se consiguieron eran acordes a lo que se solicitaba

dos coma dos millónes de euros eso era la ayuda cientos de miles dos coma dos millónes de euros exactamente es lo que se concedió a este proyecto por parte

solicitado la devolución de lo que consideramos que estaba mal ejecutado de acuerdo con las evaluaciones técnicas ahora bien no tenga usted ninguna duda que si en el procedimiento penal que está abierto

que desde luego nosotros no hemos sido capaces de detectar con los informes realizados pero si se demuestra no tendremos ninguna duda de solicitar la devolución completa a día de hoy no está demostrada y no la observamos por tanto ni discrepo ni dejo de discrepar con la administración general del estado ellos sabrán lo que tienen que hacer

y sabrán cómo han hecho el seguimiento yo puedo dar fe de lo que se ha hecho en esta comunidad y concretamente lo que se ha hecho desde spri

en administración concursal pero me lo comentaba mi compañero de consejo de gobierno que un poco más que yo sabe de este tema que precisamente es la administración concursal y el fiscal quien solicita la quiebra la calificación de quiebra fraudulenta no lo es nunca no lo ha sido

del país vasco el acreedor ni ninguno de los acreedores y no es ni tradición ni cosa por el estilo lo hace el administrador concursal y en su caso el fiscal

el administrador concursal es quien atiende al interés del acreedor pero bueno puede usted debatir con el experto después en alguna otra ocasión no es ni por tradición ni cosa por el estilo sino lo hace quien lo tiene que hacer y nunca se ha hecho es un procedimiento

forma insisto claridad nitidez transparencia todo eso existe en la evaluación de los proyectos

que no se ha plasmado en un proyecto empresarial cierto y es ahí donde ha fallado ese es el proyecto fallido

ahí está el fallo y es cierto eso es donde ha fallado y donde tenemos que conseguir mejorar el sistema para hacer ese seguimiento posterior y es lo que hemos mejorado

todos y cada uno de los informes existen y están a disposición y se pusieron a disposición y se han puesto de todos los procedimientos y no confundamos

como previamente se ha solido hacer en el caso de epsilon porque el procedimiento concursal es una cosa y el procedimiento penal establece las responsabilidades y las ha establecido en el caso epsilon veamos y esperemos a lo que va a ocurrir en el procedimiento penal abierto en estos momentos y ahí estamos personados y haremos el seguimiento evidentemente

se demuestra que ha habido quebranto más allá de eso que está tasado y definido por este gobierno

solicitaremos la devolución hasta el último céntimo pero no es eso lo que en este momento está evaluado

vamos a esperar lo que es el procedimiento penal y estamos personados y lo vamos a estar en ambos procesos el penal y el concursal eskerrik asko eskerrik asko

rojo andrea zurea da hitza gracias presidenta y buenos días a todos señores consejeros señora tapia

clara y concreta que quizás no debiera ni siquiera de tener lugar probablemente usted creería hace ya unas semanas que este tema estaba zanjado creo que hemos debatido

pero parece que en este tema nunca terminamos de tener certezas

estamos ante una ley aprobada por el parlamento vasco recurrida por el gobierno central y suspendida cautelarmente por los tribunales durante al menos cinco meses por otro lado tenemos unas declaraciones y usted misma señora consejera en las que la imposibilidad del fracking que garantizaba la ley o que pretendíamos que garantizara la ley a usted ni le ha comprometido ni le ha obligado se han continuado realizando estudios sobre una técnica ya descartada en euskadi

en el que a una cuestión planteada por alguien de los allí presentes usted dijo que efectivamente los estudios habían seguido formando parte de su departamento

firmado por el partido que sustenta el gobierno por el pnv en el que se termina de apuntalar el no al fracking aunque efectivamente había una disociación entre lo que se firmó y lo que luego se defendió ante este escenario de contradicciones entre discursos y hechos entre portavoces de un mismo partido quisiéramos plantear la pregunta que usted ya conoce

ese mandato que habla también de los estudios que usted misma reconoció que ha continuado haciendo eskerrik asko rojo andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea como bien dice señora rojo hemos debatido en todos los formatos posibles pero si hace falta

como siempre el gobierno al que pertenezco ha respondido debidamente a la obligación de cumplir con los mandatos que salen de esta cámara que emanan de esta cámara así lo ha hecho

en este momento suspendida en algunos términos como consecuencia del recurso interpuesto por el estado pero no tenga usted ninguna duda que vamos a seguir defendiendo esa ley puesto que ha emanado de esta cámara que es absolutamente soberana de decidir acerca de aquellos aspectos que le competen por tanto por una parte continuaremos defendiendo esa ley que ha emanado de esta cámara hasta el último momento y a la referencia concreta que usted hace

de acuerdo a lo que se le exige en esta cámara eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea rojo andrea zurea da hitza

una vez más estamos ante la contradicción si ustedes dicen que van a defender esa ley que aprobó este parlamento aunque ustedes inicialmente no estaban de acuerdo y además dice que por su puesto cómo no

por qué usted sigue haciendo estudios referidos a la técnica del fracking si la ley aprobada por el parlamento descartaba esa técnica absolutamente es verdad que las dudas también las tuvimos el grupo parlamentario socialista cuando

la comunidad autónoma vasca ustedes sí habían puesto alguna partida presupuestaria a través de la cual se podían seguir haciendo investigaciones y que afectaban a proyectos no solo en euskadi sino a un proyecto concretamente en burgos el proyecto angosto por tanto

nos llevan a dudar de la palabra del gobierno porque si ustedes dicen que van a defender la ley pero luego usted con la ley ya aprobada que todavía no había sido recurrida y por tanto no estaba suspendida ni cautelarmente ni de forma definitiva ningún artículo

cuando ya la mayoría de esta cámara vasca quiero decir que la mayoría de los que representamos este parlamento

si no la queremos para euskadi por qué ustedes se siguen gastando dinero público en algo que ya hemos descartado todos y que ustedes se comprometen a aceptar aunque no lo compartan totalmente

no tiene ningún sentido es seguir invirtiendo dinero de las arcas públicas

y quizás ese dinero que es mucho el dinero que se mete en eso es mucho

pero no nos podemos creer que la firma en una enmienda es real

de la técnica del fracking al mismo tiempo que decía que iba a cumplir la ley entonces no sé si nos quedaran más formatos de tener claro cuáles son las certezas del pnv entonces lo que le pregunto a usted

estudios explotación y exploración no porque no lo permite pero estudios van a seguir haciendo con dinero público eskerrik asko rojo andrea tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea espero aclararle suficiente en esta segunda intervención lo que usted me preguntaba señora rojo

yo creo que lo he comentado en más de alguna ocasión dentro de la estrategia dos mil veinte que estaba

uno de los parámetros o uno de los ejes sobre los que se trabaja y continuamos trabajando desde el ente vasco de la energía es la transición hacia las energías renovables utilizando para pasar de combustibles fósiles a absolutamente a esas energías renovables la explotación de gas y usted lo sabe y lo conoce perfectamente

se hacen diversos estudios en diversos ámbitos eso no significa que esos estudios hagan referencia a la utilización de la técnica de fracking puede utilizarse

en determinados ámbitos y en determinados lugares no utilizando

claro meridianamente claro que en esta cámara además fue aprobado por no mayoría absoluta fue aprobado por unanimidad que no se va a utilizar la técnica de fracking ni en los permisos de la comunidad autónoma y en los no de la comunidad autónoma claro y meridiano lo tenemos ahora bien

dos mil veinte seguiremos explorando si existen otras opciones si existen

utilizando técnicas no fracking podemos tener gas que pueda ser utilizado como medio de hacer esa transición energética

se pueden continuar haciendo sin grandes inversiones es a esos estudios a los que me estaba refiriendo

que a este departamento y a este gobierno le queda meridianamente claro lo que ha aprobado esta cámara eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

la negociación colectiva de ámbito estatal sigue avanzando en euskadi hau

los convenios firmados en madrid afectaron a más trabajadores vascos que los negociados en la comunidad autónoma vasca esto no es circunstancial el año pasado la tónica fue la misma

el año arranca con dos tercios de los trabajadores y trabajadoras vascas sin convenio o euskadi cede el protagonismo a madrid en la negociación de los convenios colectivos y así tenemos toda una lista de acuerdos y convenios de ámbito estatal

impiden negociaciones en otros ámbitos sin previa autorización de los firmantes en el estado y en otros casos impiden que algunas cuestiones

en ámbitos inferiores por ejemplo aquí y que en general suponen poner el marco de negociación estatal por encima

negociación colectiva vasca algunos ejemplos de ello son los convenios de jardinería el de peluquerías el de conservas

también del acuerdo marco estatal de atención a personas dependientes o el primer convenio firmado en toda la historia del metal en el estado honetaz ari gara toña jauna

hostelería conservas personas dependientes

atzetik aurre egin ahal izateko lanean jarraitzen dugu efectivamente no son buenos tiempos para las relaciones laborales

en euskadi la reforma laboral del dos mil doce supuso un cambio drástico en la normativa laboral en lo que afecta a la negociación colectiva introdujo en la ley en el estatuto de los trabajadores dos aspectos que rompieron lo que hasta entonces había sido el paradigma vigente en ese ámbito poniendo por un lado límite a la ultraactividad de los convenios colectivos y modificando sensiblemente los aspectos

la atracción de la estatalización de los convenios estatales no es más que una constatación de lo que ha pasado me consta además que los sindicatos

de esta cámara en relación sobre este asunto estos extremos unidos a una profunda crisis económica y de empleo por consiguiente

como resultado de ello tanto el nuevo marco normativo como la ausencia de convenios colectivos en vigor

se observa un aumento alarmante de la dualización contractual

con muy deficientes condiciones laborales y una situación de clara paralización de la negociación colectiva de la que tampoco son ajenos no olvidemos no solo la legislación sino también el alejamiento en la negociación entre los agentes sociales

es fruto de la autonomía colectiva de los trabajadores y de los empresarios a ellos y no a otros corresponde llevarla a cabo

poco pueden hacer los gobiernos si no se les invita pero a pesar de ello desde nuestras instituciones

se lleva a cabo creo que reconocido por todos un notable esfuerzo de intermediación y apoyo a la negociación y resolución de conflictos la intervención no solicitada de terceros ajenos a las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores desvirtúa los sistemas de autonomía colectiva que para eso son de autonomía

resultando excepcionales y sin duda contestada por los agentes sociales

sea una labor silenciosa nuestra dirección de trabajo la inspección y el consejo de relaciones laborales están

a promover y a apoyar acuerdos negociales

como toda negociación su inicio y desarrollo supone asumir y reconocer por sus protagonistas una previa situación de

contraposición de intereses que es lo que dice el estatuto de los trabajadores

y su finalización mediante un acuerdo en este caso mediante un pacto o convenio colectivo plasma el equilibrio que se alcanza entre los intereses contrapuestos en un interés reciproco no sé por qué a algunos sectores reconocer el conflicto como un elemento inherente a las relaciones laborales

cuando no es más que una mera afirmación de la realidad que es también reconocida en los textos legales

una profunda desigualdad de fuerzas de armas dice el tribunal constitucional puede llegar a impedir alcanzar ese equilibrio o dificultad enormemente el encuentro de intereses incluso el propio inicio de contactos para intercambiar recíprocamente las posturas de partida

primero para solucionar un conflicto tenemos que empezar por reconocerlo en segundo lugar tratar de gestionarlo y para gestionarlo tenemos que distinguir entre nuestras posiciones y centrarnos en acercar intereses no utilizar el poder no es conveniente utilizar el poder en la negociación ni siquiera el derecho

un acuerdo en equidad es un hecho que las alteraciones introducidas por la reforma laboral y la situación de crisis económica en su faceta de grave crisis de empleo han desdibujado el pretendido equilibrio existente con anterioridad que posibilitaba iniciar e incluso finalizar

en esta situación ante el interés que sin duda el gobierno vasco tiene en que prospere la concertación laboral por la enorme repercusión que tiene no solo económica sino también social impulsa y anima a las partes a negociar hemos planteado nuestro interés por el desbloqueo de la negociación colectiva sectorial

mecanismos de adaptabilidad de las empresas a fin de favorecer tanto su competitividad como el mantenimiento y la creación de empleo sin acuerdos políticos

no construimos confianza que es la base del crecimiento de la competitividad de la equidad y del reparto de los resultados eusko jaurlaritzak lan

la conveniencia y las estrategias ante la negociación colectiva tanto de las organizaciones patronales como sindicales que en ocasiones apuestan por la negociación a nivel de empresa

dificultan de forma importante el desarrollo de la negociación colectiva

de las pequeñas y medianas empresas en las que sin duda son mayoría

no digo que no hay que negociar a nivel empresarial pero sí que tenemos que empeñarnos a fomentar la negociación sectorial y desde luego sobre la estatalización de la negociación colectiva

por otra parte la dificultad para alcanzar en ciertos sectores mayorías representativas suficientes para otorgar eficacia general a los acuerdos

en la negociación y esto me obliga a hacer también una reflexión en voz alta

nos obliga a preguntarnos si no deberíamos aceptar no sin cierto resignación acuerdos de eficacia limitada

a los colectivos no firmantes y finalmente terminamos favoreciendo el interés general de los trabajadores que es de lo que finalmente se trata nuestra presencia

patronales por las organizaciones empresariales es evidentemente es una presencia institucional como

en todos aquellos foros que se nos invita también por parte de los agentes sociales pero eso no significa nuestro explícito apoyo a todo lo que allí se manifiesta

en lo estético los empresarios y las organizaciones empresariales organizan más actos institucionales y nosotros estamos más presentes en ellos pero no será por falta de voluntad

actos que organicen las organizaciones sindicales algunos no nos invitan cuando nos invitan estamos allí eskerrik asko

eta askotan ez dugu nahi ere erakutsi desde el gobierno vasco hemos hecho diversas propuestas a los agentes sociales protagonistas de las relaciones laborales con desigual respuesta por unos y por otros así como gestiones discretas pero de gran calado y se ha referido usted señora arrondo a la propuesta hecha por el lehendakari para mantener la ultraactividad de los convenios que fue efectivamente rechazada por confebask también por impulso de las territoriales pero digo gestiones

han tratado de impulsar la suscripción de pactos y de acuerdos también tengo que decir que no solo hemos recibido rechazos

las hemos recibido a nuestras propuestas de algunos sindicatos también las hemos recibido no digo que

tiene que ser me gustaría que fuesen de otra manera pero

en estos momentos en el seno de la mesa de diálogo social hay propuestas en debate formuladas por las partes sobre la negociación colectiva qué más quisiéramos nosotros que se aprobase y la representación del gobierno vasco en este foro

para alcanzar un mínimo entendimiento entre las propuestas planteadas por las representaciones empresariales y por la sindical ez da erraza izango eta ez da izaten ari

a pesar de su dificultad continuamos con nuestro trabajo en el referido foro

existencia que puede tener en el mundo de las relaciones laborales dada efectivamente la escasa implicación sindical en su conformación en la conformación de la mesa de diálogo social de los dos sindicatos de indudable peso representativo de nuestro país como también de cierta derivada precisamente de esa inhibición

es una pena pero a pesar de ello continuamos con la labor de buscar y propiciar el entendimiento desde luego no vamos a parar tanto con los partícipes

como con las organizaciones que rehúsan su participación por el importante efecto que tiene en nuestra sociedad nosotros sabemos que eso es importante desde luego usted

pero en el marco competencial que nos movemos donde la competencia exclusiva sobre la legislación laboral corresponde al estado al margen de actuación del gobierno vasco resulta

varios bastantes diría yo los acuerdos que se han adoptado en esta cámara en relación a la creación de los registros de los centros especiales de empleo

acuerdos además que han sido desoídos de forma sistemática por el gobierno y en una interpelación que tuvo lugar en el último pleno de control usted admitía la crítica sin más comentarios supongo que usted

para saber a qué se debe digamos el no cumplimiento de estos acuerdos

que es ya de toda la legislatura nosotros le vamos a preguntar

acerca del informe de economía social que hace el oves ya sé que me dirá que no es un informe que hace el gobierno pero el observatorio vasco de economía social tiene sus convenios con el gobierno y en principio sus informes gozan de

en ese informe que da repaso a cuál es la situación de la economía social en su conjunto

como décimos en la justificación que plantea que ha habido un incremento

en dos mil once había cuatro centros especiales de empleo en dos mil doce cinco en dos mil trece siete en dos mil catorce ocho claro

le llame la atención que no habiendo un registro de centros especiales de empleo que es un requisito habilitante para operar haya podido haber un incremento de centros especiales de empleo no deja de ser llamativo y un grupo de la oposición ante este dato lógicamente solo puede

digo que el gobierno puede escudarse en el hecho de que bueno ese informe no lo ha hecho el gobierno lo ha hecho el oves pero

en fin recoge con fidelidad cuál es el estado de la situación yo señor consejero le voy a ayudar en la respuesta porque conozco la explicación la explicación la conozco porque

en los días anteriores me llama un representante del elhabe para decirme que casualmente sabía que hoy venía esto aquí y que por lo tanto

el oves en realidad lo que hace es recoger la información que el elhabe le suministra por lo tanto yo ya le adelanto puede ser una explicación que eximiría de cualquier otra explicación o justificación

constituir una respuesta aceptable lo que hace por lo menos en mi caso es aumentar la duda porque

cuanto más difícil se convierte un objetivo en alcanzar normalmente tiendo a aumentar mi obstinación y en este punto visto que realmente las informaciones son de naturaleza tan contradictora es por lo que yo le planteo

la asociación de centros especiales de empleo y fuera de ella no cabe ninguna otra posibilidad porque claro quiero recordarle igual usted lo recuerda si le sitúo en septiembre del dos mil quince

bildu sobre reservas de contratos y bueno yo le pregunté al director de servicios porque me había parecido entender alguna explicación que había un registro de centros especiales de empleo entonces en una explicación un tanto confusa a mi entender he estado tratando en el diario de sesiones de ver en fin si entendía algo más

no son registros oficiales pero si lanbide tiene esa información cómo es que no concuerda con la que suministra el oves o con la que plantea

ya digo que lejos de despejar las dudas

me voy a la página treinta y dos del informe y dice en cuanto el número de entidades observamos una tendencia positiva durante los periodos presentados y en el año dos mil catorce

ateniendo a la distribución de los centros especiales de empleo según territorio histórico y forma jurídica

constituidas además fundamentalmente como sociedades limitadas y por otra parte es de destacar que la nueva entidad creada se ha constituido como asociación claro a mí la explicación que me dio esta persona que hablaba en nombre de elhabe es que en realidad sí comprendía que los datos podían dar lugar a la confusión

recoger en este campo los centros especiales de empleo que venían operando y que se habían

de centros especiales ex novo claro yo cuando veo esto creo que la información que me da el interlocutor

no entiendo entonces que se hable en términos de nuevas entidades creadas incremento del número de entidades es por esto por lo que le pregunto señor consejero no sé si usted tiene la información atinente a todo esto si no la tiene no importa volveremos a formularla en otro

que esta cuestión que es tan sencilla porque en territorio común se han hecho decretos para formalizar los registros de centros especiales de empleo

que ha dado el gobierno su antecesor también y eran en fin

hay un borrador de decreto para regular esto que también se consultó a elhabe pero es de octubre del dos mil catorce

en fin pero es que estamos en vía muerta una vez más yo le pregunto

por qué hay esa discrepancia entre las entidades que parece ser que han aumentado

habilitarse ningún centro especial de empleo a día de hoy pese a la insistencia de este parlamento le pregunto por eso y de paso

planteada sí al menos a qué se debe tanto retraso a qué se debe

debe de haber alguna explicación alguna explicación plausible porque es que detrás de todo esto no solo está nuestro grupo parlamentario y otros grupos es que hay iniciativas que están esperando y es por esto que aprovecho la cuestión para plantear de nuevo esta exigencia si no puede responderme a esta cuestión

pertenece su confección al gobierno por lo menos cuál es el estado de la situación

pábulo a este tipo de información que aparentemente también tiene un efecto propagandístico es que están incrementándose los centros especiales de empleo según parece no son los mismos pero que se han asociado a elhabe

seguramente no nos hemos entendido bien en las preguntas y respuestas y por lo tanto vamos a tener aquí

en parte estemos desviados los dos porque no sé si realmente hemos entendido bien el objeto de esta interpelación voy a tratar de hacerlo

lo que sí entiendo es que me hace hincapié en el no cumplimiento de los mandatos

lo tengo claro por lo menos tal y como usted lo

yo creo que más de una vez hemos dicho que aprobar un decreto no es una cuestión que lleva poco tiempo precisamente porque hay que hacer un proceso de elaboración que después diré

no no traigo aquí la información de elhabe a la que usted hace referencia

le responderé sobre la situación en la que se encuentra en este momento

registro cuál es el estado de la situación además en la justificación de motivos que leí cuando que se acompañaba a esta intervención

he entendido que no conseguí que entendiera la respuesta que di hace unos meses en esta cámara bueno le daré

en aquella interpelación le trasladé que se venía trabajando con la colaboración del tercer sector para elaborar este marco normativo que se menciona

pero tengo que recordar que los centros especiales de empleo se regulan a través de un real decreto de mil novecientos ochenta y cinco por el que se aprobó el reglamento de los centros especiales de empleo definidos en la ley del ochenta y dos

de la constitución y a falta de normativa autonómica se aplica directamente

pero tal y como usted indica este gobierno tiene previsto elaborar la normativa propia a través de un decreto que regule la creación y el funcionamiento de un registro de centros especiales de empleo

la función relativa a la calificación de centros especiales de empleo y su registro fue traspasada a la comunidad autónoma mediante acuerdo de la comisión mixta de trasferencia en el año dos mil diez en octubre

aprobado por el real decreto de cinco de noviembre en materia en un acuerdo en una materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo de empleo y la fundación profesional para el empleo que hasta entonces realizaba

lanbide asumió el ejercicio de esta función desde el inicio de su actividad aun no mencionándose expresamente se entiende incluida en la función

tres barra dos mil once de trece de octubre sobre lanbide servicio vasco de empleo

de los estatutos de este organismo dentro de la estructura de lanbide es la dirección de activación laboral la que gestiona el registro y se han ido dando pasos para la aprobación del decreto de registro de centros especiales de empleo

porque se creaba el registro vasco de centros especiales de empleo y se regulaba su calificación e inscripción

previa del texto normativo y la elaboración del correspondiente informe jurídico por parte de la dirección de los servicios generales de lanbide

de lanbide en mes de enero ya del dos mil dieciséis de este año se ha iniciado

a las organizaciones empresariales más representativas y a todas aquellas asociaciones que agrupan a los centros especiales de empleo como principales interesados en la nueva normativa aquí si cito a ehlabe y también

asimismo se solicitó informe de aquellos órganos y organismos del gobierno vasco que deben pronunciarse sobre un texto sobre cualquier decreto según los términos de la orden de inicio del procedimiento actualmente

aceptadas de manera que próximamente tiene que ser remitido al consejo económico y social para que emita su dictamen y también posteriormente a la dirección de desarrollo legislativo y control normativo solicitando su informe de legalidad

la oce la oficina de control económico del departamento de hacienda

seguimos considerando que el desarrollo de este decreto de registro de centros especiales de empleo debe ser una parte de un marco más general

las oportunidades y los retos de empleo le indique en su día y hoy se lo reitero que la intención de este gobierno es la de trabajar junto con las entidades que trabajan

sobre el empleo de las personas con discapacidad con el objetivo de poder desarrollar este marco normativo que ofrezca respuestas desde la perspectiva integral

análisis global dejo para la segunda parte algunas otras consideraciones eskerrik asko toña jauna itxaso jauna zurea da hitza

entonces con todos estos datos que

podemos albergar la esperanza de que esto lo conoceremos en esta legislatura o lo digo porque

de empleo de políticas activas hay diferentes ámbitos sobre los que intervenir pero es que este constituye

clarísimo de lo que ha sido la política del gobierno en materia de políticas activas de empleo si examinamos todo digamos toda la génesis de debates que ha habido sobre esta materia

preguntas y demás respuestas por escrito la verdad es que es un echar balones fuera es dar unas explicaciones bastante en fin formales pero muy poco consistentes porque no podemos entender señor consejero que la comunidad autónoma del país vasco

tanto hacer una cosa que en otras autonomías se ventila con mucha facilidad por otra parte el borrador que se nos suministró ya en octubre del dos mil catorce

en fin tampoco representa ninguna novedad en la regulación comparada de otras autonomías o sea no plantea ninguna cosa luego dice que un marco jurídico pero si usted ha citado el marco jurídico

entonces la pregunta sobre cuándo va a ocurrir todo esto

tenemos la impresión de que va a terminar la legislatura y este asunto que es una política activa de empleo que movilizaría recursos iniciativas que podrían inscribirse y habilitarse quizás el día de mañana podrían

pero esto del asociacionismo sabe que es libre y voluntario puede haber entidades que a lo mejor no les interés estar asociadas por mil razones pero tienen derecho a ser tratadas por igual

una petición muy reiterada de algunos colectivos es por lo que nosotros nos hacemos eco de ella y se lo volvemos a traer aquí

claro cuando lo ha citado ya la oficina de control económico he dicho puf adiós esta legislatura

porque es que realmente en esas aguas remansadas de la oce

y el gobierno utiliza como argumento ese purgatorio

en fin con el debido respeto señor consejero creo que el gobierno debe de tener alguna intención

no tiene parangón en ninguna otra autonomía hay iniciativas que están esperando lo que yo he traído hoy aquí era una cuestión de discrepancia clarísima

pero que yo le puedo citar la página treinta y dos de ese informe donde habla claramente de creación de nuevos centros y es que el mosqueo

según el informe sí aunque luego esa explicaciones que a mí me parece un tanto preventiva es decir que la respuesta del gobierno me la adelantan por teléfono a la noche

y hombre si es verdad que esto significa solo que hay centros especiales de empleo que se han asociado a ehlabe y ehlabe ha hecho esa interpretación y pone que han aumentado los centros especiales de empleo y solo ha aumentado su número de asociados bueno puede ser pero lo que yo he leído es que habla de nueva creación

y el gobierno tiene la obligación de ser diáfano de ser transparente y despejar cualquier sombra de duda si no se ha habilitado el registro no puede haber ningún incremente de centros especiales de empleo pero

ese registro aprueben de una vez ese decreto que nos están mostrando otras autonomías que son muchos más dirigentes y menos

personas con las que ustedes tienen contraído compromisos o al menos eso dicen eskerrik asko itxaso jauna

zitzaigun eta horretan gaude como he mencionado en otras ocasiones consideramos que es nuestra obligación estaría bueno faltaría más atender las peticiones de este parlamento y desarrollar

de un registro oficial de centros especiales de empleo y no vamos a parar en un proceso que está en marcha

al cementerio de los elefantes sino que termine dándole salida

sabe que acepto la crítica que se la acepté en su día y me pregunto si podríamos haberlo hecho más rápido

en el aire no estoy muy seguro sabe que no me importa responder así que no tengo ningún reparo en hacerlo

y por una razón o por otra pues no se ha hecho

el retraso ha sido indebido pero quiero insistir que la realidad es que venimos gestionando dicho registro yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que

unos muy buenos centros especiales de empleo que funcionan que están funcionando bien y que están dando el servicio que nuestra sociedad está demandando insisto que el decreto por el que se crea el registro y se regula su calificación se encuentra en tramitación

para que los centros especiales de empleo funcionen para coordinarlo con las entidades que trabajan a favor del empleo de las personas con discapacidad

no exista un registro no hay que asimilarlo automáticamente a que no haya más centros especiales de empleo lo serán

centros especiales de empleo aunque no estén registrados o aunque

pero para que no haya duda me veo en la necesidad de aclararle que los centros especiales de empleo para que puedan operar como tales

al registro de centros especiales de empleo y esto sí es importante

lo venimos trabajando con los agentes con las personas que trabajan con la discapacidad y nos consta que las entidades más importantes que realizan esta labor en euskadi

que en estos momentos gestiona lanbide y para terminar una puntualización los datos que me ha parecido a los que usted ha hecho mención del observatorio vasco de la economía social simplemente preguntando en la fuente y eso significa y dice mucho de su rigor

tal y como usted indica pero que los datos que se recogen en el informe del observatorio

son los que pertenecen a la economía social al observatorio vasco de economía social que es de lo que se encarga el observatorio vasco de economía social y los datos que usted puede estar utilizando son únicamente aquellos de los centros especiales de empleo

no son todos los centros especiales de empleo hay centros especiales de empleo que no se enmarcan necesariamente en el observatorio vasco de economía social eskerrik asko

contamos por tanto con una ley aprobada en este mismo parlamento que entiendo señora zulaika que no sea de su agrado lo entiendo bien pero como gobierno debemos hacerla cumplir como usted sabe aunque le cueste aceptarlo legebiltzar honek aprobatzen dau eta guk gobernu bezala martxan

el empleo es la prioridad del gobierno y estamos haciendo un esfuerzo por el mantenimiento de las condiciones de un empelo público de calidad

aún siendo conocedores de la diversas realidades que se pueden dar en diversos ámbitos de la contratación pública porque vemos lo que vemos considero que no se puede hablar con ligereza de condiciones laborales lamentables de las personas que trabajan para la administración pública

de la ley tres barra dos mil dieciséis supondrá un avance real en la mejora de casos incorrectos que existan

que desde el departamento que dirigimos atenderemos cuantas denuncias de incumplimiento se presenten con las pertinentes actuaciones de la inspección de trabajo actuación que desde la aprobación de la señalada ley

toda vez que las sanciones administrativas por las infracciones de orden social que eventualmente se pudieran imponer se añaden las sanciones del ámbito de la contratación pública desde el gobierno vamos a seguir trabajando en la generación de oportunidades de empleo para atajar en la medida de lo posible el nivel de desempleo que padecemos

también por supuesto en el ámbito de la contratación pública tenemos un camino de mejora lo sé haremos ese camino seguramente no tan rápido como usted requiere

y sobre la competencia normas con las que nos hemos dotado desde este parlamento y que son por lo tanto de

pasamos a empleo y en este punto tenemos la siguiente declaración que hacía usted en nombre del gobierno diciendo que era voluntad del gobierno no endurecer las condiciones de acceso a las ayudas al alquiler de vivienda por la ley del ramo por la ley de vivienda

sin embargo en la página oficial del gobierno apareció un borrador de decreto que puso en pie de guerra a tirios y troyanos se retiró inmediatamente

es por el que le preguntamos cuáles son las dificultades que imposibilitan a este gobierno

que evite que se endurezca el acceso a las ayudas para el pago del alquiler en euskadi eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

que reconoce el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada mi voluntad

de la que este parlamento se dotó se trata de un derecho subjetivo de acceso a una vivienda en régimen de alquiler siempre y cuando se acrediten unos determinados ingresos anuales y una determinada antigüedad de inscripción en el registro de solicitantes de viviendas protegidas es importante recalcar

comenzó la elaboración del decreto de desarrollo desde la entrada en vigor de la ley de vivienda con un borrador que por otro lado

efectivamente de otra manera y con mayores consensos aitortu behar dot tramitazio konplexua dela baina

erabiltzeko aukera izatea ez dituela lanak errazten a esta casi falta de regulación con un único artículo en toda la ley hemos de añadir las dificultades para hacer

entre la vigente prestación complementaria de vivienda enmarcada en el sistema de garantía de ingresos y de inclusión social y el nuevo derecho subjetivo a la vivienda y es que han pretendido ustedes integrar dos sistemas muy distintos a través de una única disposición adicional nosotros tenemos un trámite

transitorio con una disposición transitoria que nos permite seguir manteniendo las dos pero eso no puede permanecer eternamente eso se tiene que resolver definitivamente no puede haber dos prestaciones tendrá que haber solo una y usted esto
lo sabe muy bien señor itxaso eskerrik asko toña jauna

sí naturalmente tendrá que haber una ayuda pero la cuestión nuclear era

de la ley de vivienda abocaba inexorablemente a tener que endurecer las condiciones de acceso nosotros hemos entendido que no además el artículo al que usted hace referencia es una disposición transitoria es decir en tanto no se regule por lo tanto eso tiene fecha de caducidad y el gobierno puede regular perfectamente

y que las condiciones de acceso no tengan que empeorar pero convendrá conmigo señor consejero que ese amago de decreto que se presentó ha creado una alarma importante

que el mismo estaba dando lugar precisamente

harto defectuosa pues en fin da lugar a estas situaciones sin salida nosotros creemos que no de hecho el propio gobierno por ejemplo aprobó y lo poníamos en la justificación como ejemplo el decreto de compensación del copago en tres meses es verdad que tuvimos que insistir cuando quiere el gobierno

se da brío se da cera y consigue que las cosas que salgan adelante

no digo que este asunto sea fácil pero si no es fácil razón de más para no haber actuado con esa ligereza de poner un documento que claramente atentaba contra

condiciones anteriores de acceso a estas ayudas al alquiler más favorables que las que planteaba el

y eso crea sin duda una alarma importante y sobre todo

que hubiera una contestación a la ley y que planteara como se planteó en el día de ayer nada menos que su modificación que esto también es otra cosa que llama la atención porque ustedes dijeron no a la modificación pero por otra parte dicen que sí que hay que modificar realmente es difícil de saber

en este asunto nosotros creemos que las dificultades que dicen estar encontrando creo que obedecen a una lectura muy forzada el espíritu que le anima en ningún momento trata de suprimir o restringir o endurecer o menoscabar derechos que hasta ahora estaban presentes y ustedes lo saben

se recoge en sus declaraciones esperamos

otros grupos que apoyaron la ley de vivienda y sobre todo aquellas personas y aquellos colectivos que operan en este rubro acceso a la vivienda el derecho a la misma que efectivamente esa alarma pueda ser

señor itxaso publicar el borrador no fue afortunado fue un ejercicio de transparencia pero podríamos haberlo evitado pero lo que el decreto no va a hacer en ningún caso

de vivienda que establece qué órgano es el gestor de la prestación complementaria y el argumento de esta propuesta no era otro que decir dado que se pueden implantar condiciones nuevas y diferentes la ley tres barra dos mil quince las establece en la disposición transitoria

algunos colectivos que necesitan protección especial pueden quedar fuera del sistema de prestaciones que resultan necesarias en conclusión la ley de vivienda ha establecido ciertos requisitos que endurecen

de euskadi lo que hace necesaria una modificación de esta ley para posibilitar una correcta integración de ambos sistemas y no obstante le diré que la modificación que proponen no aborda en su integridad el problema sería necesario modificar por lo menos tres leyes

y sobre el que este parlamento es competente para hacerlo eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hemezortzigarren

buruz barrio jauna zurea da hitza gracias señora presidenta buenos días de nuevo señora consejera consejeros señorías

bien en el marco de la capitalidad cultural europea san sebastián dos mil dieciséis la organización presentó las claves de un proyecto expositivo denominado tratado de paz lo cierto es que es un proyecto interesante uno de los momentos

que supuestamente va a tener la capitalidad cultural que se inaugurará en unas semanas y tiene

y es que es interesante y en ese sentido se contacta con museos europeos y entendemos que tiene cuestiones importantes se basa en la figura emblemática de francisco de vitoria

que tiene formación jurídica pues uno de los padres del derecho internacional

parece que los ejes iniciales pueden ser correctos pero

preguntas del señor maneiro el señor lehendakari pero fue sorprendente fue sorprendente

cuando había referencia concretas a eta se denominaba a eta y no

a eta como el exorcismo cultura de eta fenómeno político militar y cultural es decir había una serie de reflexiones en relación con eta que nos dejó a todos sorprendidísimos

una exposición que se llamaba tratado de paz que hablase de eta como un fenómeno

era un insulto a las víctimas era un insulto a la propia sociedad

la valoración del departamento de cultura en relación con esa cuestión como miembro y la señora consejero o el señor muñoz como miembros

el lehendakari hizo algunas valoraciones pero queremos saber si se ha corregido esa cuestión tan injusta

horri buruzko inolako zalantzarik ez dagoela uste dut el texto de presentación del apartado denominado

de la citada exposición no reflejaba sin embargo dicho rechazo de manera contundente resulta evidente que dicho texto sacado de contexto específico de la exposición

por ello se actuó de inmediato mediante la rectificación por parte de la capitalidad y de la modificación del texto en cuestión este es el nuevo planteamiento curatorial

general de paz y convivencia del gobierno vasco mil novecientos ochenta y nueve

delirio y tregua lejos de ilustrar la violencia con las

que ella misma ha generado esta exposición presenta los efectos del terrorismo sobre el arte producido en el intervalo histórico que se sitúa desde las conversaciones de argel

este que acabo de leer es el nuevo texto eskerrik asko

parece ser y por lo que usted nos ha dicho

que aquello era una mala expresión una expresión insultante dentro del contexto de la capitalidad cultural

la nueva declaración en relación con esa cuestión y bueno la analizaremos desde luego lo ha leído usted rápidamente

era necesaria una rectificación si la rectificación se ha producido decididamente san sebastián dos mil dieciséis dará un paso positivo

el compromiso de la capitalidad cultural europea con la paz es indiscutible

el corazón y el alma de la capitalidad cuyo lema es precisamente cultura para convivir

rechazo absoluto al terrorismo de eta en cualquier caso de ningún modo puede considerarse que el texto original fuera enaltecedor de eta salvo mediante

el diálogo y las soluciones es de sobra conocida al igual que lo ese el compromiso incuestionable de la capitalidad y de las instituciones representadas en el patronato

y en ningún caso debe ponerse en duda dicho compromiso mediante un uso injusto e interesado de las palabras con los hechos
sacados de su verdadero contexto eskerrik asko uriarte

se lleva a cabo una prueba de acceso a los ciclos formativos de

una oportunidad de incorporarse a estas enseñanzas profesionales a las personas que no tienen el título de secundaria y no pueden entrar de forma directa sin embargo en esta ocasión la semana pasada la prueba para el acceso libre a estos ciclos

completarse en tiempo y en forma porque según parece el cuadernillo con los ejercicios en castellano y euskera que se entregó a los aspirantes incluía también

en dos mil catorce hubo también un problema en esta misma

que se repitió tras la denuncia de filtraciones de algunas preguntas por eso señora

se ha cometido un error en la preparación de la prueba un error humano como el que podemos cometer cualquiera de las personas aquí presentes es importante saber reconocerlo y aceptarlo como dijo el gran poeta británico alexander pope errar es de humanos

y rectificar es de sabios en este caso lo importante es que se supo reaccionar de manera inmediata ante el error suspendiendo la prueba y comunicando in situ la celebración de una nueva convocatoria tres días después dicha convocatoria ya ha tenido lugar

en su respuesta asumido y reconocido que se cometió un error y

personas de las cuatrocientos que se presentaron a realizar

porque estas personas con más o menos nervios los propios que acompañan a cualquiera que se presente a una prueba pues les ha supuesto un perjuicio porque han tenido que trasladarse a ese

porque han tenido que abonar un transporte para ir hasta allí

y con sus familias para la logística doméstica que

porque habrán tenido que pedir día u horas en sus lugares de trabajo en fin que

no vamos a minimizar tampoco que se haya subsanado lo que esto

bueno únicamente confiar en que no solo se sea sabio porque se ha sabido rectificar sino que además se sea eficaz en pruebas sucesivas y que

para que esto no vuelva a ocurrir y otras personas no se vean afectadas por estos fallos y errores humanos eskerrik asko ruiz andrea

y se da la paradoja de que hecho de tener unas medidas muy rigurosas respecto a la custodia traslado y entrega de los exámenes contribuyó

a la celebración de la prueba dado que los paquetes se abrieron solo unos minutos antes de comenzar la misma prueba

incluyan también las respuestas en el momento en que los miembros del tribunal se dieron cuenta del error se detuvo

a repetir la misma tres días más tarde en los mismos lugares y a la misma hora inmediatamente se procedía a publicar una resolución en la que se indicaba lo sucedido así como el proceso corrector del incidente

en su plan universitario dos mil quince dos mil dieciocho

la construcción de la facultad de medicina y enfermería como

al igual que se hacía en el anterior plan en el plan dos mil once dos mil catorce a diferencia del plan anterior

es decir el gobierno vasco solo aportará el setenta por ciento

dejando el otro treinta por ciento a iniciativa de la universidad para que la universidad consiga lograr esos recursos cómo piensa señora

abordar la construcción de esta infraestructura que todos señalamos como fundamental cuando la legislatura ya se le ha acabado

eskerrik asko mahaiburu andrea señora celaá usted misma ha dado respuesta a su pregunta me está preguntando usted por el modo en que se pretende abordar la construcción de la facultad de medicina y odontología y de la escuela universitaria de enfermería de leioa como figuraba en el plan universitario aunque como bien usted ha dicho

después de la reordenación de centros que ha hecho la propia universidad cuando esta cuestión está perfectamente recogida en el plan universitario dos mil quince dos mil dieciocho

inplikatutako gainontzeko instituzioekin lankidetzan por tanto ahora corresponde a la universidad dar el siguiente paso para que dicha facultad pueda convertirse en un futuro próximo
en la realidad que nuestra universidad y nuestros profesores y alumnos y alumnas universitarios merecen eskerrik asko

señora es que de verdad me quedo verdaderamente estupefacta vamos a ver estamos o no estamos de acuerdo

formación y la investigación en el ámbito de la salud es una prioridad de país es verdad que los hechos no suelen resistir contraste con esta afirmación habida cuenta de la escasez de recursos para la investigación que tenemos en esta materia

pero pasando esto vamos a la infraestructura oiga el otro día se presentó la promoción número cuarenta y tres

cuarenta y tres más seis años de carrera son cuarenta y nueve años cuarenta y nueve años llevan nuestros profesores y nuestros estudiantes en las aulas de lejona sin tener reparación porque todos habíamos decidido hacer una infraestructura hacer un edificio

tenemos apenas una unidad en basurto que como usted sabe tiene cinco espacios tres aulas y dos espacios adicionales y desde luego no se puede hacer allí

y usted pone una obra condicionada la nuestra era incondicionada el gobierno vasco pagaba el cien por ciento una obra condicionada

a que la universidad busque en el ayuntamiento o en la diputación el treinta por ciento del coste buenos momentos para buscar el treinta por ciento del coste pero es que además usted pone en el presupuesto del dos mil dieciséis cero coma cinco millónes de euros no hay plurianuales para el dos mil diecisiete ni para el dos mil dieciocho

un plan universitario en el cual ya la cláusula que añade me parece especialmente preocupante y dice así la cláusula bueno en el caso de que la universidad

pues mire se quiten esas cantidades ustedes las adjudican para otra cosa

esto señora esto no es un compromiso esto no es un compromiso del gobierno vasco con la construcción de la facultad de medicina como usted bien sabe

mero nominalismo esto es un compromiso que es circunstancial que está condicionado y que solo queda en el papel este gobierno señora

de las universidades del mundo no tiene ningún compromiso con la medicina con el ámbito de la salud con la construcción

quiero impulsar su actuación porque acaba la legislatura acaba el plan universitario señora acaba el plan universitario lo que significa

lo siento señora celaá usted cada día me asombra más me asombra porque el plan universitario dos mil quince dos mil dieciocho se debatió

una de ellas el parlamento vasco insta al gobierno vasco a cumplir el compromiso de la construcción de la facultad de medicina

habida cuenta de la necesidad perentoria de disponer cuanto antes del polo sanitario basurto a ver ya se debatió se debatió absolutamente todos los puntos que ha vuelto a traer usted aquí y este fue el acuerdo

señora me sorprende porque las cosas no han cambiado absolutamente nada ni en el liderazgo ni en el compromiso no han cambiado absolutamente nada y usted

cómo se gestionan los planes plurianuales de inversiones de la universidad

porque a mí me tocó elaborar el plan universitario que usted lideró

y sé cómo se pusieron las condiciones sé cómo desarrolló y actualmente también sabemos

desde el principio no ha habido ningún cambio y como le he dicho la pieza en estos momentos no está en este tejado no está en este tejado está en otro tejado y otra cosa es que nosotros desde luego tenemos un compromiso muy firme y acompañaremos a la universidad hasta el final pero un compromiso firme pero no me venga usted a marear la perdiz de que

venga aquí a jugar que ya sabemos exactamente lo que dice el plan universitario y cómo se gestiona eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

señora consejera compartirá usted con nosotros también que los delitos que se le imputan

ya hemos escuchado y he tenido la suerte de escuchar para que así conste su intervención anterior sobre este tema el problema es que no ha dicho absolutamente nada y veo que en esta ocasión tampoco me responde y me remite a lo que ya había contestado anteriormente pero yo creo que la pregunta que le hacíamos era bastante clara y es va a asumir la responsabilidad en relación con la gestión

y es que la razón es muy simple la gestión aunque la competencia sea del estado es del gobierno es suya

así que pongámonos en la materia la materia es bastante clara usted tiene

tienen una responsabilidad el consejo tendrá las que tenga pero usted y el presidente tienen una y la tienen bastante clara cuál es el problema que deviene de todo esto pues lo de siempre

las cosas por lo menos aquí empiezan a oler bastante raras

y si no corríjame el proyecto estaba presupuestado inicialmente unos dieciocho millónes de euros en madrid ustedes a través de un pacto el pacto el mismo pacto con el partido socialista obrero español en madrid para aprobar los presupuestos en las negociaciones aparte de

metieron esto también con un presupuesto de dieciocho millónes de euros qué pasa sale a la licitación baja a quince millónes de euros con lo cual ahí ya tenemos el mismo problema que antes nuestra compañera

pero en este caso que es lo que les suele pasar a ustedes con todas sus obras

que son permanentes qué está

en principio costaba dieciocho luego costó quince ahora cuesta ya casi me parece que son veintitrés millónes de euros

cuándo van a finalizar las obras y a mí que me gusta bastante el indagar y el investigar un poquillo he estado mirando cuáles son las empresas detrás de la ute y he visto que son

realmente ni idea de quién era pero fcc sí que tengo claro quiénes son y sobre todo también

se habla de sobornos y de donativos al pp por parte de esa empresa

son los que han realizado el hospital de eibar el metro donostia el parque de bomberos de ulia el parking de egia

con unos sobre costes de más de dos millónes de euros cosa que ya le denunció

que a través de los pliegos de contratación ustedes estaban obligando a la ciudadanía a pagar esos sobrecostes y es que parece ser

también los retrasos en la construcción y en la apertura están siendo considerables con lo cual tenemos a esas dos empresas pero indagando un poco más dices quién es lurgoien pues lurgoien en el consejo de administración es toda una suerte

que es una de las empresas preferidas por el pnv para construir en bizkaia

la lógica es muy fácil ustedes negocian en madrid contratos sobrecostes construcciones se lo dan todo el dinero a las mismas empresas algo sacarán de ello pero yo le digo va a hacer algo para parar esos sobrecostes va a asumir su responsabilidad
va a asumir lo que tiene que hacer eskerrik asko lópez de munain jauna oregi andrea zurea da hitza

estamos aquí hablando de la administración de un proyecto

en el ámbito de una administración por cierto la administración del estado por cierto un organismo autónomo de la administración del estado

y de no sé cuanto cosas más con las que no tengo absolutamente nada que ver

y no lance aquí cifras creo parece entiendo me imagino

hace usted ha dicho que le gusta hacer investigación sabe que la investigación también hay que hacerlo teniendo mucho cuidado de cuáles son las fuentes a las que uno recurre

a las que uno recurre y desde luego no quedarse con el primer dato que encuentra

hay que saber hay que contrastar hay que leer y hay que analizar todos los datos en cualquier caso y en cuanto a la responsabilidad o a mí

en la construcción de la lonja de pasajes y aunque ya lo he explicado antes también hay que saber un poco de administración también se puede investigar

cuáles son los órganos de gobierno del puerto de pasajes y cuáles son las responsabilidades que atañen a cada cual hablamos de un puerto de competencia de la administración general del estado

hablamos de un puerto de competencia de la administración general del estado que funciona como organismo autónomo en régimen de autonomía

controlado y coordinado por puertos del estado en el cual hay un consejo de administración de quince personas de las cuales cuatro están nombradas por el gobierno vasco

el resto de miembros del consejo de administración por si le interesa

pero le ayudo a la investigación hay cuatro vocales de la administración general del estado la alcaldesa de pasaia el alcalde de rentería tres vocales de la cámara de comercio

de la diputación foral de gipuzkoa y un representante sindical de lab como he dicho antes y por no repetirme con toda la historia se tomó un acuerdo en el consejo de administración de todas estas personas por unanimidad

ir dando una serie de pasos que aclararan todas las cuestiones que habían sido puestas encima de la mesa por un informe del interventor del estado que es el que controla a puertos del estado

en ese informe o en ese acuerdo del consejo de administración por unanimidad se decide hacer las auditorias encargando que sean supervisadas por puertos del estado por puertos del estado español

resueltas todas esas auditorias que todavía se están realizando se vaya a fiscalía eso es lo que hay

lo que yo no voy a hacer aquí y lo he dicho ya muchas veces con otras cuestiones también erigirme en juez en dictaminar es lo que hace usted pero a mí realmente no me gusta vamos a dejar trabajar a los órganos de la administración del estado y también

la modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial en este caso han estimado ustedes que es no sustancial

como consecuencia de la modificación no sustancial de la instalación la comunidad autónoma procederá a publicarla en su diario oficial